euskal talde parlamentario popularrak egindako lege proposamena tribunal vasco de cuentas

a esta tribuna para defender con pretensión de brevedad para defender

la admisión de la proposición de ley de la modificación del tribunal vasco de cuentas tengo que comenzar señorías reconociendo que esta iniciativa tiene

concretamente dos días después de la elección del señor don josé luis bilbao

diputado general de bizkaia elegido aquellos días como les digo

del tribunal de cuentas sucesivos retrasos en la tramitación de la presente proposición de ley insisto de tan solo dos artículos

que fuera tramitada y aprobada o en su caso la pasada legislatura pero hoy

y sigue siendo necesaria a nuestro juicio la modificación que proponemos del tribunal

ampliamente compartido independientemente de determinadas posiciones ideológicas o políticas pero el objetivo declarado como les digo es contribuir

en las instituciones es contribuir a generar y a recuperar mejor dicho también credibilidad e independencia en los órganos fiscalizadores de las cuentas públicas porque estamos plenamente convencidos y sabemos que este convencimiento es compartido por una amplia representación en esta cámara de que el tribunal

de cuentas públicas de que su presidencia y que sus vocales que ejercer su presidencia y ser vocal no puede ser en ningún caso un premio a una trayectoria política por muy loable que esta haya sido y tampoco puede ser

de jubilación anticipada no podemos cambiar el pasado no podemos probablemente ya rectificar errores del pasado pero sí podemos contribuir entre todos a acertar

volver a incurrir en esos errores en el futuro porque a modo de reflexión compartida con ustedes quizás

pasado reciente eran inocuas

generan falta de credibilidad en las instituciones o en todo caso

y generan un debate del que deberían de estar ajenas las instituciones o en cualquier caso los órganos fiscalizadores de las cuentas públicas de las instituciones

credibilidad y certeza certeza en virtud de la cual quien tiene encomendado el control de las cuentas públicas

y va a actuar con criterios estrictamente técnicos a la hora de evaluar qué hacemos

quienes tenemos encomendada su gestión por eso creemos que quienes formen parte del tribunal vasco de cuentas públicas ya sea en su presidencia

sería oportuno que tuvieran exclusiva mentalidad de asesores técnicos y se guiaran por criterios estrictamente técnicos y no políticos

no por haber estado en política no por haber ejercido un cargo de responsabilidad política

esto es cierto pero haber estado en política y haber ostentado una importante responsabilidad política convendrán ustedes conmigo que

sobre algunas decisiones que se puedan tomar desde órganos fiscalizadores y máxime si esta actividad política se ha desarrollado

en un breve espacio de tiempo con respecto al nombramiento de alguien

fiscalizador por eso los informes que emita el tribunal vasco de cuentas como cualquier otro órgano fiscalizador deben de ser independientes esto es algo que seguro que coincidimos y deben de tener también la apariencia de credibilidad y de independencia además de ser tienen también que parecer aquel que intervenido

y gastos o aquel que ha tenido responsabilidad política sobre los ingresos y los gastos difícilmente tendrá credibilidad a la hora de fiscalizar a la hora de controlar sus propias decisiones

de tan solo dos artículos lo que pretende es endurecer algunos podrán decir pero en cualquier caso alargar el tiempo necesario para ese tránsito de la política a los cargos de fiscalización y de control con el objetivo insisto declarado de aportar credibilidad y entre todos

la actividad la imagen la profesionalidad y en cualquier caso el acierto de los órganos fiscalizadores por todo ello solicitamos a esta cámara

seremos capaces de incorporar las mejoras que todos los grupos parlamentarios seguro que tienen oportunidad y ganas

me gustaría resaltar señor sémper la falta de lenguaje inclusivo en su proposición de ley

parlamentario vasco senador diputado foral consejero del gobierno vasco ministros empresarios etcétera etcétera

no existe y me gustaría recordarle que sí que existimos que existen ministras empresarias diputadas del congreso parlamentarias vascas existimos

y cómo no también en las proposiciones de ley y en cualquier iniciativa parlamentaria el pasado

subíamos por primera vez a esta tribuna para defender ante esta cámara

es preciso ir más allá de la mera publicidad de los documentos administrativos que trabajar en favor de la transparencia de las instituciones implica por coherencia política

con altos cargos y en última instancia contra su consecuencia más lacerante el trasvase entre política y empresa privada al que se ha denominado las puertas giratorias

del tribunal vasco de cuentas públicas y en concreto sobre si la práctica parlamentaria de su elección posibilita la politización de las mismas tiene que ver con la misma cara de la moneda si cabe todavía tiene mayor influencia en la credibilidad del sistema puesto que afecta

y contables del sector público vasco tiene que ver con la prevención de la corrupción y toda corrupción en el sector público conlleva de una manera u otra perjuicio para las arcas públicas y para el desarrollo de políticas que mejoren la vida de la gente

es necesaria que ya avanzamos que sí sino también si es suficiente para que el tribunal vasco de cuentas públicas

conforme a los valores de independencia integridad profesionalidad credibilidad inclusión cooperación e innovación que la organización internacional

considera como esenciales para los órganos del control externo

contra cualquier forma de influencia externa también

estén basados en conocimientos técnicos y científicos

calificaciones profesionales e integridad moral necesarias solo una labor fiscalizadora de gobiernos

en conjunción con un equipo y metodologías profesionales puede garantizar información sobre los resultados de la auditoría que sea imparcial confiable y objetiva

en un primer análisis podemos concluir que esta iniciativa resulta necesaria puesto que establece criterios más estrictos encaminados a garantizar mayor independencia y profesionalidad

si bien en condiciones en que los órganos de control y fiscalización de la actividad política institucional deben garantizar en su ejercicio funcionamiento y composición una independencia

sombra de sospecha sobre posibles vínculos partidistas o control por parte de los partidos políticos desde elkarrekin podemos creemos que para ser una proposición de reforma de ley

para nuestro grupo parlamentario el establecimiento de normas para que quienes vayan a dictaminar sobre el correcto uso de los recursos públicos no puedan estar condicionados por su anterior vinculación tanto si es haber ejercido algún cargo

como si se trata de cualquier otro tipo de vinculación emocional como puede ser pertenecer pongamos por caso al mismo partido aun siendo esencial no garantiza por sí sola la efectividad de los informes de los órganos de control contra la corrupción

la auditoría gubernamental permite crear transparencia hacer visible el riesgo y crear controles internos sólidos y eficaces para contribuir específicamente a la prevención de la corrupción

para este funcionamiento de estos órganos de control el primero y más importante es el de la independencia otro de los valores básicos a juicio de esta organización

sobre las cuales construyen su profesión la integridad

a través de la cooperación la innovación y la inclusión otro de los retos a los que han de enfrentarse los ocex en aras a mejorar la transparencia y el control de la gestión

a los que debe ajustar su actuación legalidad eficiencia y economía a los que recientemente se han venido a bien añadir igualdad de género

tampoco se hace referencia las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías y la posibilidad de adaptarse a una mayor exigencia y control en el tiempo y la forma en que se dictan los informes

que si es lenta no es justicia la excesiva tardanza bien en la realización de la auditoría en sí misma como en el conocimiento tanto por parte del parlamento el ente auditado o la ciudadanía en general de los informes derivados de aquella socava

de los recursos públicos y del bien común además

hubiera aconsejado pensar en una reforma que abarcase también las materias

para incrementar las auditorías operativas y priorizar las áreas de riesgo y que mayor volumen de recursos utilizan auditorías operativas que dicho sea de paso presuponen programas de actuación de las administraciones que establezcan costes y objetivos es decir indicadores

que puedan ser evaluados con el objetivo de superar el mero control de legalidad que permiten evaluar los sistemas de compras y de contratación fiscalizar los ingresos

y la racionalidad de las decisiones que sin ser ilegales no responden a la finalidad de la institución control de oportunidad y si ponemos encima de la mesa estas cuestiones es señorías porque en materia de lucha contra el fraude y la corrupción si bien actualmente los ocex no tienen competencia para imponer sanciones

en consonancia con lo expuesto también echamos en falta la incorporación de perfiles profesionales más allá de los tradicionales de derecho o economía como pueden ser arquitectura urbanismo

que no aparecen expresamente reconocidos en la propuesta de la reforma del artículo quince punto uno por último lamentamos la oportunidad perdida como sí ocurre en el reino unido de establecer entre las funciones del tribunal vasco de cuentas públicas la de ayudar al parlamento para que el gobierno garantice los servicios públicos a los que está obligado a prestar así como la de ayudar a ahorrar recursos ahorro que por cierto

el pasado quince de diciembre decíamos que una parte importante de la sociedad vasca ya no pone la mano en el fuego por sus representantes políticos ni por las instituciones que estas gobiernan

para que desde el ámbito político y administrativo todas las instituciones y las personas con altos cargos nos impliquemos

y avanzadas con el doble objetivo de que la ciudadanía recupere su confianza en las instituciones y de que la administración vasca en su conjunto avance de forma decidida en la defensa del interés público y del bien común pues bien esa misma argumentación es perfectamente aplicable a los miembros del tribunal vasco de cuentas

pueden asegurar la rendición de cuentas transparencia buena gobernanza así como la utilización racional de fondos públicos y la eficiencia de los esfuerzos contra la corrupción

y global que amenaza las finanzas públicas el orden jurídico la prosperidad social

e impide reducir la pobreza en consecuencia nuestro grupo parlamentario va a apoyar la tramitación de la modificación de ley que presenta el grupo del partido popular aunque entendemos que no es lo suficientemente ambiciosa y desaprovecha la ocasión de entrar en una reforma de mayor profundidad porque quizás al menos esa impresión nos da en el fondo de esta iniciativa solo subyace

del partido al que usted señor sémper pertenece eskerrik asko eskerrik asko arana andrea aurkako txandan

agradecer el apoyo de elkarrekin podemos a la tramitación de la iniciativa

deficiencias detectadas tendremos oportunidad ahora en la propia tramitación

está injustificado y es injusto y se lo tengo que decir mire nosotros no tenemos que lavar la cara de nada

podemos ir con la cabeza bien alta en relación con nuestro compromiso con la sociedad vasca con los ciudadanos que nos han votado y con los que no nos han votado y desde luego con el ejercicio honesto y honrado de la política espero que usted después de unos cuantos años

los socialistas hoy como hace año y medio consideramos oportuno abordar la reforma no solo de esta ley sino de las que afecten a los organismos que dependan de este parlamento

que había quedado pendiente de la legislatura anterior no entraremos hoy porque no corresponde a los contenidos exactos de la propuesta estamos en una toma en consideración lo que hoy comienza es un camino parlamentario que no debería de alargarse demasiado en el tiempo y que esperamos que culmine con acuerdos de largo recorrido

ya reflejamos nuestro parecer en forma de enmiendas a las dos proposiciones que se presentaron en su momento para la reforma de la ley que regula el tribunal vasco de cuentas públicas lo que sí constatamos y nos alegra es que el partido popular

coincidía también con las pretensiones con las que eh bildu trajo también la suya en su momento

era una cuestión de cuotas de partido cuando lo que nosotros dijimos es que la cuestión era responder a cómo se puede mejorar el funcionamiento del tribunal cómo podemos evitar conflictos de intereses o sombras de sospecha y cómo adaptamos

de la ciudadanía de este siglo estamos hablando del tribunal de cuentas de quien está encargado de fiscalizar las administraciones públicas y todos coincidiremos en la necesidad de reforzar las condiciones de imparcialidad de experiencia y de conocimiento técnico de sus miembros no significa exigir asepsia política todos tenemos una forma de pensar no solo los políticos la tienen los jueces los policías los médicos los profesores lo que se pide a quienes tienen encomendados el servicio público de la justicia de la seguridad de la salud o de la educación es que ejerzan sus funciones sin estar condicionados por su proximidad o vinculación algún partido así lo dijimos en su día y vemos que el partido popular ha introducido esa corrección

que cumple su mandato cuando nosotros ya hayamos terminado el nuestro y que tampoco se haga al calor de candidatos que nos gusten más o menos a unos y a otros porque los debates oportunistas sobre cuestiones de fondo a veces nos trastoca los discursos

y el de los socialistas es claro queremos actualizar las instituciones queremos poner las al día y no seguir actuando por inercias de normas que hace dos o tres décadas

esto es algo que conviene que entiendan también aquellos que se incorporan a la vida política porque admitimos fallos en nuestras normativas pero que en su día estas normativas tuvieron un sentido y que lo que corresponde en este momento es actualizarlas en esta casa en esta cámara hemos ido dando pasos yo lo he recordado y alguien de los que me ha precedido en la legislatura pasada aprobamos a instancia del grupo socialista una ley de incompatibilidades y de conflicto de intereses que es muy exigente con quienes cargos públicos es una ley eliminada perdón pensada para eliminar sospechas sobre la actividad política pero sin querer convertir en sospechosos a quienes ejercen la actividad política a los políticos ahora tenemos la oportunidad de eliminar sombras

esta labor aquí la cuestión es que los ciudadanos nos reclaman eficacia que quieren tener confianza en sus instituciones en la gestión en la prestación de los servicios y la atención

y también en cómo se fiscalizan las cuentas de las distintas administraciones que esa es la función que tiene el tribunal vasco de cuentas públicas

negoziazioak non interes partidisten arabera ematen diren evitar evitar la designación de los miembros del tribunal en base a intereses partidistas o a cambio de otras designaciones en otros ámbitos se lo recordaría a la señora castelo o al señor pastor que está saliendo en estos momentos del hemiciclo josé luis bilbao josé luis bilbao

de la adjunta del ararteko ese es el cambio de cromos que se hizo en la anterior legislatura beraz hori hori saihesteko

sartzen genuen gure lege proposamenean hautaketa prozesua gehiago zehaztearena josé luis bilbao tragar el sapo de josé luis bilbao

a cambio de un puesto de la adjunta del ararteko bigarren gaia bigarren gakoa lege proposamenean ezartzen genuena

venía a decir la señora quiroga en ese pleno hori ere izan behar da lege honen helburuetako bat independentea

una el objeto y otra el sujeto llama mucho la atención el sujeto de esta proposición de ley que precisamente quien en el tribunal de cuentas del estado tiene a una exministra mariscal de gante que precisamente

a un patrono de faes para el tribunal de cuentas

de valencia en la audiencia provincial de valencia como presidente podríamos hablar del tribunal constitucional podríamos hablar del consejo general del poder judicial presente esta iniciativa nos llama la atención también el objeto el fondo del asunto porque

presentación de la iniciativa anterior a esta iniciativa poco más de un año las razones y los requisitos que se establecen y las razones para la inelegibilidad

que habiendo presentado esto aquí y habiendo tenido durante los últimos cuatro años una importante mayoría absoluta que les daba total autonomía de decisión en madrid no lo hayan hecho también en el estado hori esanda guk

del voto en contra y aunque suene raro se lo voy a decir no por estar en contra de la tramitación que nos parece bien nos parece oportuno que se tramite esta iniciativa y de que podamos tener una oportunidad de debatirlo quizás con más serenidad pero

tomar decisiones de cómo hacerlo y hemos creído que la mejor manera de manifestar también desde ya

ya conocía pero a favor de la tramitación aunque vayamos a votar en contra y sobre todo no utilizar el punto de explicación de voto para no incurrir en los errores de la señora gorospe que se mete con alguien y luego no hay posibilidad

tenga la oportunidad de rebatirlo en cualquier caso asistimos a un debate cuyos argumentos conocemos lo hemos debatido en la pasada legislatura ampliamente y en numerosas ocasiones

en el debate del desencuentro en el que hay posiciones particulares absolutamente legítimas absolutamente razonables y como digo archiexplicadas pero que al final nos llevan a donde

político sin duda pero también basado en el desencuentro de los símbolos y cuáles son los símbolos que creemos que mejor nos pueden representar o que mejor pueden representar

de nuestro acervo cultural y es una de las señas de identidad fundamentales por no decir la más importante que tenemos es probablemente

y es algo motivo de celebración motivo de orgullo y motivo sin duda de unión entre los vascos y yo le decía la pasada legislatura

porque es patrimonio de los que lo hablan y de los que no yo creo que esto es algo que tenemos también que intentar

el euskera desde luego es patrimonio del conjunto de los vascos tengan la suerte o la fortuna de hablarlo o por circunstancias muy variadas

de todos pero en cualquier caso es que la realidad es que este debate adquiere protagonismo a partir del año

no había estado entre las preocupaciones de los partidos políticos representados en esta cámara la celebración como tal de un día de euskadi no había formado parte de nuestra agenda de la de nadie probablemente

celebración particular cargada de simbolismo pero particular y de parte

en torno a una decisión democrática a una decisión avalada por una mayoría aplastante de vascos que configuran nuestra comunidad autónoma por primera vez en su historia como un sujeto político que es la promoción del estatuto de autonomía de gernika sobre el cual hay opiniones y esto

sobre su cumplimiento su desarrollo hay opiniones particulares pero lo que es una realidad objetiva

hay un documento político que nos configura como sociedad políticamente hablando es la primera vez en nuestra historia que se articulan

votada en referéndum por los ciudadanos estatuto de autonomía del que emana la legitimidad a este parlamento del hecho de que hoy podamos estar debatiendo sobre estas cuestiones

y que dota de competencias a este parlamento como nunca en la historia de euskadi habíamos tenido un nivel de autogobierno del que nunca en nuestra historia habíamos disfrutado

al lehendakari a las leyes de las que nos dotamos en definitiva

un punto de encuentro sustentado también en renuncias un punto de encuentro en una sociedad heterogénea diversa plural esto en su acepción positiva

menos positiva una sociedad también enfrentada en política en símbolos y en sentimientos un estatuto de autonomía

consigue un punto de acuerdo y un punto de entendimiento refrendado por los vascos

que con respecto al futuro de esta comunidad política tengamos unos y otros nos parece que es un acontecimiento

conmemorado por lo tanto nuestro no no es un no al día del euskera como el día de euskadi

a una posición que creemos que tiene una relevancia política diferente y que es la que merece ser reconocida

y es la que vamos a seguir defendiendo también en la tramitación de la presente proposición de ley muchas gracias eskerrik asko

un argumento que se me ha pasado antes y que a raíz de escucharle a usted bueno no es que se me haya pasado se me ha ocurrido a raíz de escucharle a usted

tengo serias dudas entendiendo que su proposición

tiene un interés blanco no el que coincida con navarra no tiene nada que ver y no estoy convencido creo que la idoneidad de tener un día específico para el euskara el día internacional del euskara podría verse empañada o tapada por la de euskadi yo creo que nosotros creemos que

merece un día específico solo para la celebración del euskara y solo para eso creo que

usted compartirá conmigo que acabará con el día del euskara porque quedará tapado por el día de euskadi es algo que creo que podremos reflexión seguro
en la propia tramitación muchas gracias eskerrik asko sémper jauna eztabaida amaitu denez

mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi hay cuestiones que por el mero hecho de ser

van convirtiéndose en costumbre algunas incluso terminan convirtiéndose en una especie de tradición y este es un clarísimo ejemplo de ello euskadi no cuenta a día de hoy con un día que conmemore su existencia su razón

en cambio cuenta con una tradición que con el paso del tiempo se está

el debate sobre la instauración del día de euskadi señorías yo soy nuevo en esta cámara tan nuevo como el más nuevo y sin embargo este debate me resulta viejo me resulta recurrente

en el mismo sitio y pasan las legislaturas y vuelve

y sin embargo no avanzamos nunca cambia nada ojo esto no quiere decir que nosotros no veamos la necesidad de compartir un día de celebrarlo como compartimos a su vez también un proyecto común como sociedad oraingo honetan berriro eh bildu legebiltzarkide taldeak

euskaldun ohi murriztea dela uste dugu ahora bien si el motivo real es la búsqueda de una celebración conjunta o que coincida con el de la comunidad foral de navarra entiendo perfectamente

y la causalidad de querer hacer coincidir el día del euskera con el día de euskadi pero no se hagan trampas al solitario porque allí es una cuestión

de coincidencia con el día del euskera

como el día de euskadi requiere de un amplio consenso de un amplio acuerdo entre diferentes que precisamente ponga el acento en lo que nos une en lo que coincide incluso reconocimos cuando se debatió en esta misma cámara por boca de jesús eguiguren en el año dos mil diez que no existía un consenso en torno

sea la de propiciar una nueva fecha que represente a la mitad más uno de esta cámara para que dentro de unos años otra mitad más uno la fecha de ese día por eso apostamos por encontrar un nuevo nexo que nos una verdaderamente a todos señorías hemos mostrado nuestro compromiso expreso a someter al criterio de los ciudadanos y ciudadanas aquello que todos los aquí presentes seamos capaces de acordar

que nos una y que nos aleje de divisiones de enfrentamientos un proceso y objetivo que será posible si todos asumimos además de nuestras voluntades las voluntades de los demás y la garantía de todo lo que decidamos pase por respetar el ordenamiento jurídico vigente ese proceso debiera de acabar en referéndum y será ese referéndum donde la ciudadanía vasca respalde y apruebe

entre nosotros y ese puede ser un extraordinario motivo para celebrar para celebrar la unión el nexo de lo que nos une como día de euskadi el otro día escuchaba a un miembro del grupo proponente ponerse como objetivo temporal para tener ese texto ese nuevo estatuto de autonomía el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve

va a ser casualidad que terminemos celebrando el día de euskadi un veinticinco de octubre voy finalizando entendemos que la mejor solución es encontrar

mientras tanto nos parece bien que por ejemplo sigamos celebrando marcando en rojo aunque no sea una fiesta oficial en el calendario

que los vascos nacionalistas y no nacionalistas socialistas anarquistas republicanos abertzales nos pusimos conjuntamente a colaborar a pesar de ser

muy diferente en la tarea común de la justicia la protección de los vascos y vascas de un trabajo compartido entre diferentes

queda claro nuestro posicionamiento nuestro voto contrario ojala que el tiempo pero sobre todo nuestra capacidad de acuerdo traigan a este país un nuevo estatuto de autonomía
que refrendado por la ciudadanía en la urnas sea motivo de celebración para todos nosotros eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna egibar jauna zurea da hitza

gracias presidenta sin solución de continuidad como acaba de señalar mi compañero eneko andueza

si damos una oportunidad a encontrar lo que nos une en torno al autogobierno y si lo hacemos preguntar a los ciudadanos si lo avalan y en ese caso encontrar algo que celebrar de forma compartida reabrimos la puerta de una ponencia

empezamos hace cuarenta años a construir la comunidad política de euskadi desde un compromiso de distintas fuerzas nacionalistas no nacionalistas

los vascos y también un pacto con el resto de españa un acuerdo de convivencia política que asumiera nuestras peculiaridades y asumiera también la solidaridad

sin lugar a dudas a la mayor época de progreso en igualdad que hayan vivido

pero hace ya tiempo es verdad que muchos empezamos a ver que ese pacto necesitaba ser renovado hacía falta porque una generación da por natural la sanidad la educación pública la ertzaintza la existencia de e i te be

como si no fueran resultado de la responsabilidad que decidimos asumir los vascos con las competencias que teníamos a nuestro alcance no han llegado aquí todos estos derechos

pero sobre todo porque creen que los actuales instrumentos no dan respuesta a sus inquietudes también veíamos que ese pacto tenía que ser renovado porque cuando lo cerrábamos no estábamos en europa no previmos que había intereses concretos que defender allí ni qué parte de nuestras capacidades no nos eran hurtadas por un malévolo estado

y de los vascos con el resto de los españoles habíamos adquirido también un nuevo pacto con el resto de los europeos otra de las necesidades de la actualización era que un pacto

estaba siendo cuestionado por acción u omisión por unos y por otros por los eternamente insatisfechos que creen que un acuerdo consiste en que te dé la razón en todo y también por los eternamente tentados en volver al punto cero

que negaba la descentralización del propio estado blindaje social nuevas realidades seguridad jurídica de las decisiones todo esto es lo que teníamos pendiente de revisar y todo esto sigue pendiente los socialistas creemos que las grietas que podamos percibir no pueden ser utilizadas por nadie como argumento

construimos hace cuarenta años lo que durante décadas defendimos por encima de quienes lo quisieron destruir en la pasada legislatura se realizó

empezamos la tarea de buscar la conexión entre las conclusiones de cada cual porque estamos convencidos de que existe un gran territorio común sabiendo todos que las posiciones máximas de cada uno no se pueden pretender que se acepten como trágalas por los demás pero es que además en esta legislatura se ha incorporado un nuevo grupo a esta cámara que desconocemos como quiere hacer esa actualización deben tener su oportunidad para que recabe las opiniones que consideren y presenten las conclusiones que les parezcan

y a partir de entonces esta ponencia comenzará la tarea de verdad la de que cada cual no solo defienda el modelo de su partido esto es lo más fácil sino que decida

de los demás la posición de los socialistas es conocida está registrada por escrito en esta cámara creemos en el autogobierno estuvimos

y en los que lo hicieron posible también en mil novecientos setenta y nueve y en todos los que han desarrollado los servicios públicos y los derechos sociales sobre los que tenemos competencias también hemos estado en la denuncia y en la búsqueda de alternativas a quienes han querido cercenar servicios derechos y competencias

y a las nuevas necesidades de esta sociedad queremos que como en el pasado el futuro de euskadi se base en un nuevo acuerdo entre diferentes para dar satisfacción a lo que necesitan los ciudadanos no a lo que necesitan los partidos queremos un nuevo estatuto más solidario más justo

una nueva carta de derechos y obligaciones que blinde derechos y blinde también las garantías de pluralidad que nos defina como miembros de una misma comunidad

con esa vocación conocida con concreciones que ya están registradas en esta cámara volvemos a estos trabajos de la ponencia también con una idea tan clara como en la anterior que lo que hagamos el resultado de nuestros debates se debe de adecuar al ordenamiento jurídico vigente porque sinceramente

se quiera levantar la voz en algunos momentos de nada valdrán los esfuerzos que podamos hacer si carecen de seguridad generarán frustración eso sí y no les valdrían de nada a los ciudadanos y lo que todos tenemos que plantearnos es si acudimos a este foro a reproducir nuestras tesis

de los programas electorales de cada cual o si lo que hacemos es acudir a encontrar herramientas seguras para dar respuesta a lo que nos demandan quienes nos han votado no nos va a asustar ningún debate ni vamos a reunir ninguna propuesta

dan cuenta de cientos de discusiones sobre asuntos como nación derecho a decidir solidaridad con españa relaciones con navarra derechos históricos presencia en europa ahora lo que importa es saber si estas posiciones conocidas por todos

como resultado posiciones compartidas entre diferentes para dar respuesta a nacionalistas y a no nacionalistas que conformamos esta comunidad y que esas

además tengan la certeza legal suficiente de que no van a quedar varadas en un tribunal y la certeza social suficiente como para que los vascos lo refrenden

quienes le representamos por lo tanto lo importante no es poner ni plazos ni fechas

ni tampoco marear la perdiz estamos comenzando la legislatura tenemos recorrido andando lo que está por comprobar es lo queremos llevar cada uno de los partidos aquí representados los socialistas proponemos el punto de encuentro y además siguiendo los procedimientos acordados para hacerlo

garantía de la utilidad de este trabajo muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

hoy tenemos en la mesa un debate con un objetivo muy claro

que tiene que ser el foro donde todos los partidos podamos hablar de todo sin límites en relación al autogobierno y la actualización del estatus político de euskadi sentando unas bases mínimas para que todas las fuerzas políticas de este país podamos

debatir y ojalá también llegar a acuerdos desde luego esa es nuestra más firme intención es por ello que primero sí que me gustaría expresar pequeña satisfacción ante el acuerdo que hemos alcanzado de cara a la constitución de esta ponencia en la que como ejemplo de lo que será seguramente

negociación de cara a la mejora de nuestro autogobierno hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo

un buen precedente de cara al desarrollo de los trabajos posteriores que se van a dar en este espacio pero que sí que es cierto que nos hubiera gustado que hubiera sido más amplio no ha sido posible pero bueno sin ningún tipo de drama estamos seguros de que

en esta ponencia continuando las sociedades democráticas modernas basan su funcionamiento colectivo en una serie de acuerdos fundamentales que regulan los términos básicos de la convivencia en términos políticos muchos de estos acuerdos acaban materializándose en textos legales como pueden ser las constituciones

o incluso algunas que ni tan siquiera pasan por convertirse en textos legales en nuestro caso en mil novecientos setenta y nueve

llegamos a un acuerdo que se materializó entre otros en el estatuto de gernika un acuerdo que ha posibilitado

un notable nivel de autogobierno y que supuso también un pacto entre diferentes sensibilidades políticas no obstante y reconociendo todo lo positivo que ha traído este acuerdo

interpretaciones y reinterpretaciones protagonizadas por todas las fuerzas que lo sustentaban desnaturalizando en muchos casos el mismo espíritu del propio acuerdo es imposible no volver la mirada por un lado a la loapa o a leyes de base abusivas pero también por

en otros ámbitos tampoco es posible no citar el impacto que la violencia de motivación política tuvo la consecución de este acuerdo así y excusado todo esto en la actualidad y treinta y siete años después de la aprobación de un acuerdo que tomó rango de norma fundamental su desarrollo sigue estando incompleto estos pactos sociales

con una vida útil limitada su pervivencia depende de multitud de factores pero el principal debería de ser la voluntad manifestada por la ciudadanía de renovarlo

esta característica lejos de ser algo excepcional o dramático debe de ser vivida como algo natural en nuestro caso treinta y siete años después de aquellos acuerdos una nueva generación de vascos y vascas quiere alcanzar un nuevo pacto

más transversal entre las diferentes identidades nacionales que componen nuestro país y que ponga en valor los aciertos pero también los errores del tiempo pasado en esta ponencia deberemos atender esa necesidad ciudadana y política de renovar nuestros acuerdos de convivencia

se ha abierto un tiempo político muy diferente al de mil novecientos setenta y nueve

a nuevos retos un nuevo tiempo que está caracterizado por la demanda

un contexto de necesidad de regeneración institucional y una crisis económica que ha precarizado las bases materiales de la mayoría de la ciudadanía por lo tanto abrir este debate

implica alcanzar una serie de acuerdos mucho más amplios en materias social e institucional sobre todo porque negar estas otras dimensiones

simplemente significa reservar para quienes gobiernan la resolución implícita de estas cuestiones imponiendo una determinada arquitectura institucional y un determinado modelo de construcción social desde elkarrekin podemos siempre hemos sido claros al respecto de lo que el autogobierno significa para nosotros siempre hemos señalado claramente que el autogobierno no es

hablar de autogobierno también significa ampliar el foco más allá de lo territorial y poner encima de la mesa el blindaje de los derechos sociales la arquitectura institucional de euskadi

hablar de participación de transparencia o de rendición de cuentas en los últimos tiempos han sido los múltiples los movimientos sociales e intelectuales

la incompatibilidad entre desigualdad social y democracia la formulación en positivo de esta idea que esta ya fuertemente arraigada en la conciencia de la ciudadanía es buscar el blindaje de los derechos sociales en los acuerdos de convivencia es buscar

en el caso de lo que hoy tenemos aquí una igualdad entendida en un sentido amplio abarcando tanto el ámbito de la desigualdad socio económica como

o de todas las opciones y condiciones personales en la última legislatura se han producido avances en la consideración del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo anteriormente se produjeron otros muy significativos

por decenas de miles de vascos y vascas exigiendo un ingreso mínimo en casos de necesidad hoy como ayer necesitamos abrir un debate sobre la pertinencia y viabilidad de la implantación de una renta básica en euskadi partiendo de la renta de garantía de ingresos ya existente y el fruto de ese debate incluirse en estos acuerdos así como otras cuestiones vinculadas a garantizar una educación pública de calidad laica e inclusiva o una sanidad pública

este principio político debe ser consagrado en el pacto social como un objetivo prioritario de la acción de nuestras instituciones

entre otras cuestiones por blindar muchas de nuestras conquistas en nuestros textos de rango legal más alto máxime cuando hemos visto

algunos gobiernos y no solo en madrid han tratado de arrebatarnos estos mínimos de dignidad fruto de la injusta gestión de la crisis que se ha hecho estamos aprendiendo no con poco sufrimiento

cuando asegura una serie de servicios públicos y derechos sociales a su ciudadanía consideramos que esta máxima debe ocupar la centralidad en el nuevo pacto social y político del que nos dotemos nunca más una euskadi sin su gente porque frente a las propuestas indefinidas de nuevo estatus de algunos que esconden meros traspasos de competencias elkarrekin podemos queremos confrontar una propuesta alternativa pensada en dar respuesta a los intereses y necesidades de la mayoría social hablaba ya ahora del avance social hablemos también del avance democrático

del reconocimiento de euskadi como nación y partiendo asimismo de la voluntad inequívoca de convivir

el siguiente paso natural es entender que el nuevo estatus territorial que alcancemos deberá contar con la adhesión de una amplia mayoría social y además de una mayoría transversal en lo identitario esta es otra máxima que entendemos que es aceptable para todas las opciones políticas si camina de la mano

de decidir de la ciudadanía vasca todos estos son factores que posibilitan que una propuesta de nuevo estatus compartida entre diferentes

anhelos territoriales más ambiciosos sino para que sea un espacio cómodo de encuentro y convivencia

en este sentido desde elkarrekin podemos entendemos que en estas claves y en este momento concreto es posible e incluso recomendable que abordemos el debate del estatus territorial

un estatus territorial que dada la propia naturaleza de los pactos sociales

ni a permanecer indefinidamente sino que es el acuerdo al que aquí y ahora

habiendo tomado en cuenta los aciertos y errores de nuestro pasado más inmediato partiendo

nuestra pluralidad actualmente existente sin traumas y en una

no puede permanecer indiferente ante la voluntad de un territorio de modificar su estatus territorial si esta voluntad ha sido manifestada democráticamente y apoyada por una amplia mayoría

para que todos los proyectos políticos puedan llevarse a cabo por decirlo de otro modo no hay un techo legal a la voluntad democráticamente expresada por la ciudadanía

del nuevo pacto social se trata de abrir la senda de un avance democrático sustancial para las aspiraciones de una mayoría social que quiere disponer de capacidad para decidir independientemente de la opción por la que optasen una hipotética consulta esa capacidad de decidir

es capaz de responder a la voluntad ciudadana dando garantías a todas las partes si bien desde una perspectiva estrictamente competencial el parlamento vasco no puede promulgar una ley de estas características los partidos vascos

a todos los proyectos políticos democráticos presentes en nuestra sociedad respondiendo a las premisas contempladas al comienzo

siempre partiendo de la base de que la voluntad ciudadana y política debe encontrar un soporte jurídico y no al revés

de una consulta en la que la ciudadanía pueda refrendar el nuevo pacto social que se acuerde por lo tanto expresamos aquí nuestro deseo para que esta ponencia sirva para lo que ha de ser su único objetivo la creación de unas bases de actualización de nuestro actual autogobierno y estatus político

y ha de utilizar para mejorar la vida de sus gentes y para reflejar las demandas democráticas básicas

es verdad llevamos debatiendo sobre este asunto de una u otra manera con una u otra intensidad mucho tiempo decía el señor pastor cuarenta años bueno

probablemente sí porque en paralelo al desarrollo económico

fundamentalmente el estatuto de autonomía con carácter periódico el discurso nacionalista lo acompañaba ese desarrollo económico y social sin parangón

el partido nacionalista vasco o el conjunto de los nacionalistas jalonaban sus intervenciones

creo que fruto de la esencia propia del nacionalismo que si deja de reivindicar

todos lo podemos entender desde un punto de vista intelectual

de hecho lo intentó el señor ardanza fíjense

y ahora parece aunque pocos se lo crean que lo va a intentar el señor urkullu también

con una intensidad renovada hemos participado en una ponencia creada al afecto para reflexionar sobre el desarrollo del estatuto de autonomía

y compartir una reflexión o las bases para su hipotética actualización sin apriorismos porque también convenimos entonces que podía haber una posición

en virtud de la cual se detectara o conviniéramos que no hacía falta una reforma

pero la conclusión después de cuatro años fue la que ya sabíamos prácticamente todos que íbamos a tener y es que no nos aportamos nada especialmente nuevo

de cuatro años constituimos esa ponencia

sirvió para repetirnos lo que ya sabemos que opinamos unos y otros para escucharnos no es malo escucharse pero es verdad que a efectos prácticos poco

hoy algo nuevo por enmendarme sabemos que el partido nacionalista vasco por boca de su portavoz apuesta por un pacto basado en el derecho a decidir y que su socio de gobierno parece que dice otra cosa y

puede generar algún tipo de incomodidad en la relación

a lo largo de estos últimos cuatro años y esto es para los que no tuvieron la suerte la fortuna de participar en estos debates si no hay ironía por mi parte en estas palabras

escuchamos a expertos también no juristas de reconocido prestigio a otros que tenían un prestigio quizás menos reconocido

escuchamos a ex políticos a ex representantes a ex gobernantes incluso

a contarnos sus experiencias y algunos con cierta osadía a decirnos qué es lo que teníamos que hacer

de los últimos cuatro años también los grupos políticos allí representados tuvimos la oportunidad de compartir

qué visión tenemos del desarrollo del autogobierno y qué opinión tenemos de manera genérica pero lo hicimos

de las que nos dotemos toda esta energía toda esta energía

empleada o no habida cuenta dónde estamos hoy es la que dedicamos

años últimos algo energía dedicada a un tema

no tengo la sensación no tenemos el pulso al menos nosotros de que este debate suscite una angustia desmedida en el conjunto de la población vasca pero

cuatro años dedicados a esto aunque los problemas vayan creciendo por otro lado

que tenemos que afrontar vayan por otro y hoy hoy

de esta cámara la reedición de esta ponencia venga segunda txanda

en la ponencia después de la experiencia de décadas señor pastor pero

y es que creíamos que no es necesaria una reforma del estatuto de autonomía en cualquier caso que no es urgente

y esta posición las sustentábamos y argumentábamos en dos motivos fundamentales

una capacidad de autogobierno no explorada y no exprimida que creemos que tenemos unas herramientas de autogobierno que todavía pueden dar muchos frutos igual que las han dado hasta ahora que podemos seguir exprimiéndolas y aprovechándolas que creemos que hay una tarea ingente por abordar como es modernizar y mejorar la administración y el servicio que prestamos al ciudadano

retos demográficos retos de cómo hacer para mantener el estado del bienestar

que probablemente son previos a abrir estos debates estos melones que creemos que hay reformas institucionales en la propia euskadi que articulen

y que no son debates menores y no son debates que precisamente se van a cerrar en debates parlamentarios de una mañana

las diputaciones nuestras capitales cómo hacemos para hacer más ágil la administración más transparente también y más eficaz en el servicio que presta al ciudadano este era uno de los motivos fundamentales que creemos

y el segundo de los motivos porque habida cuenta de lo que hemos escuchado de unos y otros

creemos que nos meteríamos en un lío señor lehendakari creemos que en este momento con las amenazas

con las incertidumbres que tenemos como sociedad pero no la vasca

creo que esto habida cuenta de las posiciones de unos y de otros ahora en euskadi

de imprevisibles consecuencias creemos que es mucho más positivo en este momento apostar por la colaboración por la interdependencia

qué nos une en lugar de qué nos separa y aprovechar insisto la potencialidad del estatuto de autonomía y creemos

o en cualquier caso nos puede llevar a una situación que ya hemos vivido en el pasado y en cualquier caso

necesitamos pedimos imploramos políticamente que traduzcan

lehendakari que nos traduzcan qué es la bilateralidad

por eso pedimos un texto articulado por eso pedimos una concreción mire señor lehendakari

porque no le consideramos precisamente un descerebrado todo lo contrario a lo mejor le consideramos una persona equivocada pero desde luego no un descerebrado

sabemos que el partido nacionalista vasco mira con interés

pero le queremos decir una cosa también señor lehendakari

generalmente sale mal y no sale mal para los partidos políticos o para el debate en esta cámara

los cálculos sobre lo imprevisible tienen desarrollos imprevisibles y tienen también desenlaces imprevisibles y sobre esto tenemos que tomar buena cuenta

tenemos que esforzarnos en buscar los puntos de acuerdo y de entendimiento entre vascos fundamentalmente pero también nuestra relación con el resto de españoles y ese debería ser nuestro objetivo porque lo contrario es jugar con fuego pero si aun así

en desarrollar una hoja de ruta y en desarrollar una posición política que algunas veces el señor egibar la manifiesta de una manera yo creo que con mucha claridad otras veces otros dirigentes del partido nacionalista vasco la modulan otras veces el señor lehendakari nos dice otra cosa

es legítimo pretender una reforma de la norma también es legítimo pretender

pero lo que se debe decir es qué se quiere cambiar y para qué porque si no es así no estaremos ante un debate estaremos ante una estrategia de parte que es la estrategia del partido nacionalista vasco a la que nos llevan a todos una estrategia que puede ser dilatoria o una estrategia que puede consistir en aparcar este debate en una comisión en el parlamento para no tener problemas con mi socio de gobierno
o para no desvelar las verdaderas intenciones amaitzen joan sémper jauna termino ya señora presidenta por eso nuestra enmienda

después de tantas décadas de debate después de estos últimos cuatro años de reflexión quien quiera y quien tenga una propuesta de reforma

que la presente para que podamos debatirla que presente un texto articulado sobre el cual los partidos políticos representados en esta cámara nos podamos manifestar porque si no estaremos jugando a la estrategia del pnv no estaremos provocando un debate no estaremos facilitando un debate para reformar nuestra norma estatutaria estaremos jugando su estrategia señor lehendakari y usted tiene plena legitimidad para tener una estrategia ustedes tienen plena legitimidad para aparcar debates

es a reclamarles claridad de una vez por todas porque este debate identitario en virtud del cual un día se dice una cosa aquí en esta tribuna y otra en la sede del partido

el texto que se somete hoy a votación a juicio de euskal herria bildu no es suficiente

en crear una ponencia sobre autogobierno pero nos preocupa que en la justificación de la propuesta haya una serie de conceptos que se mire por donde se mire

desde el comienzo el rumbo de esta ponencia porque puede dar lugar a que en algún sentido la ponencia nazca coja las mujeres y hombres que nos sentamos en este parlamento somos representantes de la ciudadanía de araba bizkaia y gipuzkoa y a ellos nos debemos y a nadie más

defender son sus necesidades las que debemos defender y los trabajos de este parlamento en esta ponencia tienen que ser dirigidos siempre mirando el bienestar de esos ciudadanos y ciudadanas y siempre tiene que estar

de la ciudadanía a la que representamos en ese sentido digo no tengamos miedo a la democracia no hay ningún motivo para que en este país no estén abiertas todas las posibles opciones de futuro

esatea nuestra voluntad por avanzar en el autogobierno es real no tengan ustedes ninguna duda euskal herria bildu lo va a hacer de forma seria porque quiere llevar a este país al lugar que se merece y ese lugar no es otro que

pidan las gentes de este país es algo que sobre el papel al menos defienden también la mayor parte de los miembros de esta cámara ahora hace falta que además de sobre el papel y en las campañas electorales lo veamos en el día a día y en los hechos euskal herria bildu podemos y euzko alderdi jeltzalea partido nacionalista vasco el quince de diciembre fuimos capaces

de la llamada a declarar por el tribunal superior de justicia de cataluña de la señora

tienen legitimidad democrática para decidir su futuro teniendo que ser el límite lo que la ciudadanía exprese y decida democráticamente

sí gracias presidenta me felicito por el tono cordial que se ha mantenido por parte de todos los grupos políticos

a podemos que creo que ha puesto de su parte una parte importante de inteligencia política pero yo creo que todos debiéramos de huir

de caer en debates nominalistas hoy se trata pura y simplemente de constituir y poner en marcha la ponencia de autogobierno de nada más no de hacer un relato de lo que cada uno políticamente entiende que le interesa discutir porque si no hubiéramos llegado a un punto del pleno en el que la aprobación de la ponencia hubiera tenido unos doce folios

los blindajes sociales la reforma constitucional de españa la unidad de españa en fin

motivo ni el interés de la aprobación de la discusión del día de hoy sino la constitución de la ponencia de autogobierno y la ponencia de autogobierno decidirá en su seno

todos aquellos asuntos temas cuestiones que entiendan que son

para garantizar el bienestar y el futuro de los ciudadanos vascos que creo que de eso estamos hablando no de dar satisfacción a las aspiraciones políticas de cada uno de los grupos de esta cámara porque en fin yo también podría haber estado interesado en que apareciera la reforma constitucional en sentido federal o la desaparición de los sociales y la emancipación de las clases trabajadoras como aparece en nuestro programa máximo verdad

para nuestros electores y para nuestros militantes y afiliados pero no para el conjunto de la sociedad vasca a la que se supone que debemos por lo tanto huyamos de esos debates nominalistas porque es muy legítimo lo que pueda defender cualquier partido político también ustedes señora iriarte pero también lo que defiendo yo o cualquiera de los demás

lo duradero lo útil para la sociedad vasca es que seamos capaces de encontrar un gran punto de encuentro que nos satisfaga al menos mínimamente a todos

mediante pactos y si no hay un gran pacto esa nación que se dice defender no existe y por lo tanto se hace imposible

y su existencia y señor sémper también con todo el afecto es verdad como usted dice que hay otras tareas pendientes que abordar además de la reforma del estatuto por supuesto

en esa ponencia de autogobierno como la reforma institucional interna de la comunidad autónoma por ejemplo también puede ser por qué no objeto de la ponencia de autogobierno

la discusión en la ponencia sobre la reforma del estatuto no evita que se puedan plantear otras cuestiones pendientes que las hay evidentemente en la sociedad vasca no usted hacia una referencia a la necesidad de un texto articulado yo

los análisis previo el contraste de opiniones las conclusiones que cada uno de los grupos establezca la apuesta en común si es posible de todas ellas

va a acabar con la solicitud de elaboración y redacción de un texto articulado que tendrá que llegar a la ponencia de este parlamento y tendrá que ser discutido lógicamente

qué es lo que se quiere hacer qué es lo que se quiere conseguir de qué forma y con qué instrumentos no y volveremos a tener una discusión sin duda gratificante yo lo único que pido a todos los miembros de esta cámara es que nos demos una oportunidad de explorar

de alcanzar un territorio común donde todos podamos encontrarnos eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

solo sirven si se abren entonces

del reino yo creo que es hora de aportar en la búsqueda de mayor consenso posible pero sin vetos eta gero

josean y agradecer también a los grupos que hemos considerado acordar esto

cuando uno se ubica fuera de la realidad lo que pasa es que ya la sociedad misma le ubica fuera de la realidad son ustedes ya la quinta fuerza

y eso sucede porque uno se va alejando cada día cada día más y más y más de lo que realmente sucede quizás y evidentemente la mayor preocupación que tiene en este momento la ciudadanía vasca es el empleo pero eso no quiere decir que no sea

y desde luego efectivamente tenemos grandes retos y para esos grandes retos

y la mejor manera de conseguir y de construir las grandes herramientas que necesitamos para esos grandes retos que requiere el desarrollo

el autogobierno y por supuesto que nadie bloquee de ninguna manera el desarrollo de ese autogobierno eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

tenga usted cuidado con algunas cosas se lo digo con todo el afecto porque en la política es así es imprevisible unos vienen a asaltar los cielos y se quedan en once diputados que no está mal pero de ahí a asaltar los cielos pues hay una gran diferencia y luego además hay que tener la humildad necesaria en política porque claro la pregunta que cabría hacerse es hombre

señor martínez tiempo al tiempo y vayamos viendo cómo se desarrolla la política pero créame usted afortunadamente

y a uno le dan una vez el respaldo electoral y otras veces no por eso

en todo caso más prudente de verdad con todo el afecto y no es un consejo

el señor pastor se quejaba de que había por parte de eh bildu cierto debate nominalista no hay otro debate que haya sido nominalista señor pastor es que no salimos del debate nominalista y eso es lo que queremos

queremos que se nos diga claramente qué es lo que se pretende probablemente a ustedes ahora eso no les interese somos conscientes también y sensibles

que hay que dar contenido a grandes frases a frases grandilocuentes y a expresiones políticas que parece que lo llenan todo pero que hurtan y evitan la posibilidad de debatir porque no conocemos el contenido

por eso le decía yo qué es el nuevo estatus que ya se nos anuncia además

encargar a expertos en la materia que redacten un texto qué es usted lo sabe sabrá lo mismo que yo o sabe algo más pero no lo sabemos realmente

no sabemos cuál es el contenido político de esto

y puede haber una estrategia dilatoria no lo afirmo puede haber una estrategia dilatoria

a un partido determinado que convenga a una coalición de gobierno determinado pero que no aporta nada a la sociedad vasca por cuanto

y lo que pedimos es la concreción lo que pedimos es tener la posibilidad de debatir sobre un texto articulado poder enmendar

otros dos años más de reflexión otros tantos años para esperar un texto articulado de otra legislatura más con las quejas con el pie en pared con vamos a hacer no sé

por cierto señor erkoreka los pies en pared o tenemos tres piernas

en el suelo mantener el equilibrio porque no tiene usted tres piernas

vamos por otra senda cambiemos el guion del partido nacionalista vasco es a lo que les invitamos a todos

no aporta nada a la sociedad vasca en esta cámara debatamos ya sobre cosas concretas señor lehendakari eso es lo que le estamos pidiendo que podamos posicionarnos sobre una propuesta concreta de quien cree que es tan esencialista

muy esencialistas son esencialistas en los conceptos que transmite son esencialistas

la voluntad de defender los intereses de esta tierra porque nosotros hemos sido elegidos por vascos igual que usted por vascos y vascas igual que usted

con la misma legitimidad que tiene usted sentado ahí la tienen los parlamentarios del partido popular nosotros no nos debemos a nadie más allá de que nuestra conciencia nuestra opinión política y el respeto que tenemos a quienes nos han votado y a quienes

vascos y vascas no le quepa la menor duda ese esencialismo del partido nacionalista vasco

yo creo que ha quedado un poco demodé y creo que hay que evolucionar señor egibar y además señor egibar

todo el día por activa o por pasiva en positivo

especialmente malo pero todo el día hablando de españa de rajoy y del gobierno de la nación superemos esta dialéctica y termino con esta invitación al partido nacionalista vasco superemos esta dialéctica esencialista

a vascos un poco más vascos y a vascos un poco menos vascos en función de las posiciones políticas que defendemos superemos esta dialéctica

nosotros vamos a participar en esa ponencia con ilusión renovada bueno igual me he venido arriba con lo de ilusión vamos a participar en esa ponencia con interés renovado

que nos concreten qué es lo que quieren hacer y vamos a intentar también aunque en esto señor pastor nos quedemos solos vamos a intentar también

pero que poco aporta a la sociedad vasca muchas gracias eskerrik asko sémper jauna amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria

porque si usted algo me ha subrayado es que tenemos que atender al ordenamiento jurídico

mientras los demás nos dábamos crema en la playa y cuando la señora rosa parks se sentó en el asiento de los blancos también estaba transgrediendo el ordenamiento jurídico pero se sentó y cuando miles de vascos

en algunos casos pagaron con penas de cárcel por no ir al servicio militar al que les llamaba la armada española también

nuestro hijos no sé si nuestras hijas estarían en ese mismo brete no hacen

eta con el manos libres en marcha podremos estoy segura trabajar en común y dar pasos

de álava bizkaia y gipuzkoa puedan decidir sobre su futuro

lanbideren plan erreforma ekartzeko eta hemen legebiltzarrean eztabaidatzeko para ubicarnos en la realidad bajar

hoy debatimos una nueva iniciativa del partido popular que afecta a un asunto que nos afecta a todos que preocupa a los ciudadanos en definitiva

no es la primera vez y seguramente ojalá fuera así fuera la última pero seguramente como digo no será la última que tengamos que traer a esta cámara una iniciativa

la pasada legislatura debatimos en múltiples ocasiones sobre esta cuestión sobre lanbide el servicio vasco de empleo su ineficacia

y la necesidad de modificar la normativa de las ayudas sociales para que estas ayudas llegaran realmente a las personas que lo necesitan también hay que recordar que en este parlamento se dio la espalda a miles de ciudadanos que planteaban abrir el debate en esta cámara sobre las ayudas sociales

en la primera sesión ordinaria de este parlamento en el primer pleno ordinario decidió plantear esta iniciativa otra vez una iniciativa para modificar la normativa de las ayudas sociales a través de una proposición no de ley tenemos que decir que en esa iniciativa se llegó a un acuerdo por parte de los grupos con representación en esta cámara donde el partido popular se abstuvo porque había una indefinición

de atenuar la responsabilidad de un gobierno cuando la responsabilidad de un gobierno en la gestión de un servicio como el servicio vasco de empleo pues

que no se ha asumido como se tenía que haber asumido y por eso hoy constatamos un fracaso en lanbide en el servicio vasco de empleo en la gestión de las ayudas sociales sino en lo que tiene que ver

también de las personas que están recibiendo una ayuda social porque el objetivo

tenía que haber sido dar una oportunidad a las personas que perciben una ayuda social una prestación económica

y darles una oportunidad de que no se cronifiquen en el sistema como está sucediendo actualmente y digo que nos abstuvimos

hablaba de un pacto de promover un pacto luego hablaba de hacer un diagnóstico luego hablaba de atraer ese diagnóstico al parlamento para fijar un procedimiento

a una normativa es decir estamos dilatando y que este gobierno asuma las responsabilidades que le correspondan en una materia que este gobierno nos ha dicho en reiteradas ocasiones también al comienzo de esta legislatura tanto en la comparecencia el otro día de la consejera de empleo y asuntos sociales como en la primera comparecencia y en el discurso de investidura del lehendakari que el empleo

no puede ser el empleo la prioridad de un gobierno cuando el servicio vasco de empleo está como está yo creo que les animo a que hagan un ejercicio muy sencillo porque es que muchas veces

es que los calificativos son

negativos son todos peyorativos esto es lo que ha conseguido este gobierno después de la transferencia de las políticas activas de empleo con la gestión que se ha hecho

planteamos de nuevo un debate que tiene que ver con un problema que está en la calle que preocupa a los ciudadanos como he dicho al principio de mi intervención planteamos que el gobierno elabore un plan de reforma de lanbide

un plan que lo guarde en un cajón sino que elabore un plan lo traiga a este parlamento y se debata en este parlamento en un plazo de cuatro meses creemos

varios meses una vez que el problema está reconocido

creemos que ese plazo es suficiente para realizar este plan y que se corrijan

y se ponga definitivamente este servicio al favor de la empleabilidad lanbide es una auténtico desastre y eso hay que reconocerlo y eso está ahí y por lo tanto

no valen medidas que han terminado en fracaso sino que realmente hay que coger el toro por los cuernos y este gobierno tiene que asumir

porque es su responsabilidad la responsabilidad del partido nacionalista vasco que durante cuatro años sabiendo y conociendo la situación de lanbide no

de lanbide y creemos desde el grupo popular que los ciudadanos vascos tenemos derecho a tener un servicio público vasco de empleo

que cumpla los objetivos que tiene encomendados en relación a la empleabilidad como he dicho anteriormente tanto de las personas desocupadas como dar esa inserción laboral esa oportunidad

una ayuda social en definitiva los ciudadanos vascos tenemos derecho

vasco de empleo que funciona de forma eficaz y eficiente eso desde luego pasa inevitablemente por arbitrar un sistema justo solidario y sostenible por garantizar que las ayudas lleguen a las personas que realmente lo necesitan por evitar situaciones abusivas irregulares y de fraude que las hay y las estamos conociendo todos los días que no haya receptores de la rgi que delincan

por cometer delitos o condenados por cometer delitos conectar definitivamente la percepción de una ayuda social con la empleabilidad dar a los perceptores esa oportunidad que se merecen de salir de una vez por todas del sistema y que no se cronifiquen

y que se le dé una oportunidad de desarrollar un proyecto de vida por medio

que se subsane también definitivamente la gestión de las prestaciones económicas el otro día nos daba la propia consejera el dato ciento cincuenta y cinco millónes de euros de cobros indebidos

sociales y de estas prestaciones económicas por lo tanto la inacción de este gobierno del gobierno del señor urkullu durante los últimos años y especialmente

lleva a la necesidad de volver a plantear hoy aquí este debate lanbideren porrota

eta enpleguaren politika aktiboak kudeatzeko zerbitzu publiko bezala no vale señora consejera venir aquí el otro día

a este parlamento para explicar las líneas generales de su departamento durante los próximos cuatro años y traernos aquí la misma retahíla de propuestas y de compromisos que ya trajo

años es que hay que decirles a los ciudadanos vascos y a las ciudadanas vascas que hemos perdido

años es que el señor aburto nos hablaba de definir un modelo de lanbide nos hablaba de interrelación con los agentes que intervienen nos hablaba de priorizar los programas de lanbide nos hablaba de desarrollar programas específicos para jóvenes nos hablaba de acercar lanbide a las empresas de que la tasa de intermediación de llegaría al cinco por ciento y estamos en un tres coma veintisiete por ciento según el dato que nos dio usted el otro día

de consolidar lanbide como un sistema de empleo moderno eficaz consensuado integrado con otros agentes nos hablaba el señor aburto hace cuatro años de dar una atención personalizada

de definir planes individualizados de establecer sistemas de colaboración con otros agentes

qué han hecho ustedes durante cuatro años para que nos planteen las mismas cosas que nos plantearon hace cuatro años que es que ni siquiera nos plantean mejoras o continuar con esas propuestas nos plantean esas propuestas esas iniciativas como si lanbide naciera ahora

hemen egongo lanbideren erreforma eztabaidatzen ustedes señorías señores del gobierno han perdido cuatro años cuatro años de enorme trascendencia y definitivos para consolidar precisamente un empleo estable y de calidad que es precisamente lo que hoy

en su enmienda de transacción si hubieran hecho los deberes como les decía anteriormente y asumido su responsabilidad no estaríamos hoy aquí planteando este debate no estaríamos planteando hoy

andadura un plan de reforma de lanbide un plan integral de reforma de lanbide que se revise y se retoque lanbide de arriba a abajo si ustedes hubieran asumido su responsabilidad no estaríamos hoy planteando aquí este debate

anteriores del departamento el consejero y el viceconsejero nos decían que las empresas pasan de lanbide

no se les ocurriría ir a lanbide no estamos hablando de meros retoques de simples parches

gobierno del partido nacionalista vasco se ha reconocido la inutilidad de lanbide no valen meras operaciones de maquillaje para atenuar

su fracaso señores es un asunto que tenía que haber sido una prioridad absoluta para este gobierno ya la pasada legislatura

como digo que se ha constatado el fracaso de lanbide nada menos que el servicio público

de todos los vascos de la empleabilidad del principal objetivo que tenía que haber sido el principal objetivo y la principal preocupación de este gobierno palabras huecas no nos digan que el empleo es la principal preocupación de este gobierno no nos lo digan porque a los hechos nos remitimos y el principal instrumento que tenemos para impulsar el empleo para consolidar la recuperación económica en euskadi que hemos ido a rebufo de las medidas que se han tomado por el gobierno central del partido popular tenemos un instrumento propio una herramienta para haber podido hacer algo o mucho más de lo que ustedes han hecho por ello les exigimos que hagan una reflexión profunda en esta materia que rectifiquen su actitud durante tantos años y en definitiva que asuman su responsabilidad nosotros planteamos en la iniciativa

a esta cámara para su debate en el plazo de cuatro meses creemos que es un periodo de tiempo bastante

teniendo en cuenta que esto no es nuevo teniendo en cuenta que el señor consejero en la comparecencia el señor toña el predecesor de la señora artolazabal

nos decía que estaban hechos trabajos en una comisión técnica y que los próximos días

y se tendría un documento por lo tanto señorías creo que ustedes siguen perdiendo el tiempo y con esta enmienda de transacción

pero creemos claramente que se queda corta hablan de seis meses

pero ustedes empiezan ahora a establecer conversaciones con agentes que tengan algo que decir en relación a esta

hablamos de seis meses que lo traerán luego a esta cámara para su debate si así obviamente lo estima la junta de portavoces creo que es un periodo de tiempo

creo que además el plan habría que traerlo sin más al parlamento vasco para su debate

echo en falta llegado este momento alguna asunción de algún tipo de responsabilidad y algún tipo de rectificación porque no estamos hoy aquí planteando

servicio público en la gestión de las ayudas sociales y en poner como decía un servicio fundamental si se considera que el empleo es una

como obviamente no nos satisface pues no la votaremos

gracias también al partido popular por permitir la acumulación de estas iniciativas

bere gobernu akordioan dion bezala la sensibilidad y el compromiso con las necesidades básicas de las personas deben seguir siendo el principio esencial de la acción de las instituciones públicas garantizar los servicios públicos esenciales y las políticas sociales son los ejes sobre los que asentar la cohesión y la calidad de vida en euskadi a ver si a lo largo de estos cuatro años no se olvidan ustedes de esto desde luego nosotras estaremos aquí

como venía diciendo hablar de lanbide es hablar de un servicio público que según la ley

estable y de calidad sabemos que lanbide a día de hoy no cumple ese objetivo y sabemos también

a la altura de la ciudadanía a la que debe atender el gobierno

proceder a la reforma y modernización del servicio público de empleo dotándolo de herramientas que le permitan reforzar las funciones de orientación formación e inserción en el mercado laboral pues bien señoras y señores del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi aplíquense a su buen propósito

al resto de grupos de esta cámara escuchando también a los colectivos sociales que llevan años denunciando su pésima gestión de este servicio público aunque algunas

palabra y sobre todo antes de hacerlo antes de reformar lanbide

no es bueno reconozcan que no está funcionando como debería que no está sirviendo al objetivo del empleo que la ley le encomienda

tienen la responsabilidad porque a día de hoy lanbide tiene muchas carencias que a nosotras desde elkarrekin podemos

con lanbide en su condición de servicio vasco de empleo y las temáticas que ese nombre conlleva y las que tienen que ver con las gestión de la renta de garantía de ingreso entendemos que aunque la reforma se vayan a abordar por separado

como ya sabrán partimos de que utilizar el servicio vasco de empleo para gestionar el derecho a la garantía de ingresos de la población fue un error y lo sigue siendo

a día de hoy y si no pregunten ustedes a quienes a día de hoy se les siguen reclamando pagos indebidos del año dos mil doce consideramos

pero también y sobre todo porque el derecho a la garantía de ingresos tiene que estar separado del derecho al empleo sabemos no hace falta que nos recuerden ustedes que la ley se modificó

pero nosotras tenemos argumentos y razones que señalan que fue una decisión equivocada y por lo tanto debemos defender la necesidad

porque la garantía de ingresos es un derecho de la población efectivamente de la que pueda acceder a un empleo

vamos a seguir generando ciudadanas de primera y de segunda con nosotras desde luego no cuenten para esto la gestión de la rgi dentro de lanbide entorpece y visto lo visto hace daño y supone de nuevo

porque aunque el derecho esté condicionado al acceso al empleo los problemas de gestión del servicio hacen que en la práctica lanbide en lugar de mejorar las condiciones y el acceso al empleo de la ciudadanía vasca

hacen un uso responsable de los recursos con lo discutible que esto es desde un punto de vista ético aunque al comienzo de la intervención ya lo he dicho los problemas de lanbide no solo son

tiene una segunda dimensión como servicio público de empleo porque cómo pretende cambiar lanbide

hace unos días una bolsa de empleo en la que pretenden al menos visto el temario que los orientadores laborales y las orientadoras laborales

entendemos que las personas que se dedican a la orientación laboral en lanbide deben tener unas funciones claras y no condicionar una cosa a la otra creemos que esto es un juego bastante feo y que puede dejarse en libertad a mucha gente

a muchas personas y mucho menos a las que tienen dificultades especiales para acceder a un mercado laboral cada vez más precarizado y que ofrece miseria a cambio de flexibilidad

que es facilitar el acceso al mercado laboral y ofrecer a la ciudadanía vasca

a día de hoy lanbide dedica ingentes esfuerzos a controlar a las personas y las obliga a acceder a formación o empleo sin atender a sus intereses o necesidades bajo la amenaza de que no hacerlo

creemos que la labor de un servicio público no es hacer esto es ofrecer oportunidades con mayúsculas y escuchar a la población y es que para poder garantizar el cumplimiento de los fines de lanbide

sin consenso sobre cómo hacerlo porque en este tema tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en facilitar un proceso de reforma abierto a la ciudadanía y discutido en esta cámara

y en esta línea entendemos que la reforma pasa por garantizar una evaluación previa que sea compartida y en la que las personas usuarias del servicio también participen

quienes dicen que sus familiares no se les pasa por la cabeza apuntarse a lanbide para encontrar trabajo reconociendo la ineficacia en su papel de acompañante en esta búsqueda de empleo

a las que se les atiende de cualquier manera y a las que se les invita u obliga según el caso a aceptar formaciones que no les interesan o aportan

o sin garantizar su capacidad de conciliar tal vez ellas sepan decirnos cómo hacerlo mejor en segundo lugar asegurar la participación de los agentes sociales porque sin ellos

llevan ustedes tiempo desoyendo a la ciudadanía que está diciendo sistemáticamente que las cosas no funcionan las y los representantes de esta cámara somos una pata de la mesa el gobierno

tenemos el deber de hablar con las personas que utilizan el servicio con las que prestan servicios complementarios con las que estudian con las que ya desde la calle nos recomiendan otras formas de hacerlo en tercer lugar es imprescindible que esta reforma incorpore una mirada de género porque sabemos que la desigualdad es una realidad y que un servicio como este ha de tener una mirada sobre las mujeres con doble o triple jornada con doble o triple precarización

las que reflejamos en nuestros rostros la pobreza entendemos que se abren oportunidades en una sociedad cada vez más envejecida para desarrollar

y entendemos que esa responsabilidad no puede y además no debe caer sobre las mujeres y no pueden ni deben estas

siempre de una forma más precarizada y peor valorada que otros empleos hay que transversalizar las tareas de cuidados y hay que acabar con la división sexual del trabajo y de los cuidados también por ejemplo en las ofertas formativas que condenan siempre a la misma población a los mismos nichos de empleo porque el papel del servicio público de empleo es fundamental en esta tarea

y por lo tanto nos parece fundamental que esto se contemple en el compromiso que hoy adquirimos para reformar lanbide

y con ellas como sujetos de derecho que contemple de forma transversal y en todos los ámbitos

por contemplar además de esto la garantía de eficiencia y eficacia en el servicio el setenta y cinco por ciento de parados y paradas de euskadi

sigue siendo la política pública peor valorada y la mayoría cree que no sirve para encontrar empleo porque entre otras cosas la propia plantilla de lanbide viene denunciando de manera reiterada

las que viven itinerarios de inclusión social las mayores de cuarenta y cinco

siguen teniendo un porcentaje mayor las jóvenes con empleo es más esclavo temporales y precarios

en fin podríamos seguir así pero no terminaríamos esta reforma debe garantizar una oferta de empleo de calidad calidad con mayúsculas porque los datos dicen que la mejor del empleo en euskadi es de forma no de fondo tenemos una tasa de

por ciento lo que se ve claramente agravado en el caso de las personas menores de veinticinco años

si bien estos datos como en otras cuestiones no son los peores del estado vemos cómo las trabajadores y trabajadores vascos pierden poder adquisitivo desde el año dos mil doce

a la cabeza del estado en condiciones precarizadas para ello es necesario un sistema fuerte que apueste por empleo de calidad y eso pasa sin duda por más y mejor inspección por más y mejor control de las empresas y de las condiciones que estas ofrecen a las personas trabajadores pasa también por una mejora de los convenios colectivos y de la relación con la representación de los trabajadores sabemos que ustedes han decidido para este gobierno separar

que nos parece inapropiado porque quita la capacidad de acción estratégica y global a un tema que según ustedes es prioritario para su gobierno

porque hoy estamos abordando esta propuesta de realizar una reforma sin que el gobierno haya dicho nada

no se haya hablado del presupuesto que se va a dotar a lanbide y por último entendemos que es fundamental que se apueste por el reparto del empleo existente y por una búsqueda de relevo generacional así como reciclaje profesional

sabemos que es indispensable apostar por un buen servicio de empleo un lanbide público

en el centro un lanbide con recursos suficientes y que con una buena dirección se convierta en una herramienta eficaz para que cualquier persona que necesite encontrar empleo

desde elkarrekin podemos nos hemos dejado la piel en conseguir transaccionar esta proposición porque

la que lo está pasando mal la que va a la oficina de lanbide sin tener respuestas necesita

necesita que lanbide les dé respuestas necesita que sea un servicio digno por eso

por eso hemos estado días y semanas hablando con los grupos intercambiando textos y buscando acuerdos esta transacción no es la mayor gloria de ninguno de estos grupos este acuerdo es para la ciudadanía

edo kasu honetan adostasun zabal batetara ailegatzea tenemos que reconocer que tenemos un problema un problema serio en forma de servicio vasco de empleo en la medida que tenemos una herramienta que no ha sido útil que no ha sido

no ha sido útil para los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas descabalgadas del mundo laboral con una voluntad clara de volver al circuito de empleo pero que sin embargo

a su situación personal un problema que ha sido objeto de debate incluso en esta misma cámara y que además

capítulos de mejora o propuestas de mejora que sin embargo no se han cumplido en absoluto un hecho que pone de manifiesto la necesidad de una reforma integral

sustancial entiendo yo del compromiso del compromiso expresado por parte tanto del gobierno

para abordar sin dilación la reforma y modernización de lanbide para los socialistas vascos la inclusión social y la lucha contra la pobreza requieren del máximo esfuerzo por parte de las instituciones un esfuerzo unidireccional a garantizar la igualdad de oportunidades para los ciudadanos y ciudadanas de este país un esfuerzo compartido ilimitado focalizado también en la capacitación de las personas y su promoción en el acceso al mercado laboral especialmente

que por uno u otro motivo están más alejadas de dicho mercado lanbide debe ser ante todo y sobre todo una garantía una garantía y una herramienta

los medios para salir de su situación debe ser una herramienta de orientación un elemento tractor en la puesta en marcha de instrumentos de formación para el empleo una plataforma de apoyo al emprendizaje y por supuesto debe de ser el ente que gestiona las prestaciones económicas para los perceptores de la renta de garantía de ingresos

la activación social a través de la inclusión en el mercado y es ahí donde debemos de focalizar en gran medida los objetivos de esa reforma a día de hoy el noventa por ciento de los recursos de lanbide están volcados en la rgi existe por tanto un déficit real

el servicio vasco de empleo lanbide y que no es otro que la intermediación laboral y la búsqueda del acceso a un empleo para sus usuarios lanbide

por eso es necesario afrontar sin dilación este debate por eso es necesaria que ponga el énfasis en la conversión real de lanbide en un servicio de empleo donde la intermediación la orientación y la formación

los socialistas vascos apostamos firmemente por un servicio vasco de empleo que sea universal que sea integrador que sea activador un servicio que mantenga la vinculación de las prestaciones económicas de carácter social

es la activación para el empleo la mejor manera de salir de la exclusión social y de manera muy especial en estos tiempos de crisis esa debe de ser la base para afrontar esta reforma una necesidad de reforma

mucho más acentuada fruto de la crisis y del notable incremento del número

servicio es preciso por tanto y más que necesario abrir este debate

y económicos recuperando el espíritu de diálogo de consenso con el mismo consenso que se hizo posible la puesta en marcha de lanbide y que desgraciadamente

tan efectivo como a todos nos hubiera gustado esta reforma tampoco puede obviar la dimensión local de las políticas de empleo debemos afrontar esta reforma también desde el ámbito local cercano

cercanos a nuestros ciudadanos y ciudadanas como son las entidades locales los ayuntamientos las agencias de desarrollo comarcal debemos compartir

definir compromisos criterios de actuación especialmente en aquellas zonas que peor lo están pasando en aquellas comarcas y localidades donde el desempleo azota con mayor violencia debemos equilibrar todas y cada una

los puntos negros del mapa laboral vasco el objetivo de esta reforma debe centrarse de manera especial en un acompañamiento de mayor intensidad a los

aquellas personas que por sus circunstancias requieren de un mayor compromiso por parte de las instituciones lanbide debe ser una garantía en el acompañamiento de la búsqueda de empleo

actualmente se encuentran sin empleo y especialmente para aquellos que abandonaron de forma prematura sus estudios para las mujeres haciendo hincapié en el aprendizaje permanente

desempleados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años focalizando el mayor esfuerzo en aquellos que se hayan visto arrojados al desempleo en la última etapa de su vida laboral como consecuencia de expedientes

de empleo y por supuesto a todos los perceptores y perceptoras de la renta de garantía de ingresos que se encuentran en el circuito de mejora de su empleabilidad o incluso en aquellos trabajadores y trabajadoras que aún siguen necesitando a pesar de tener un puesto de trabajo

de sus condiciones laborales unas condiciones que les permitan vivir dignamente sin necesidad de acogerse a ningún tipo de prestación lanbide debe ser por tanto

de impulso para la incentivación de la contratación y muy especialmente para los colectivos que necesitan de la intervención directa de las instituciones como debe ser también elemento tractor en la puesta en marcha de planes formativos como vía directa de la consecución de empleos cualificados y de calidad es necesario que lanbide lidere la puesta en marcha así como el desarrollo de un sistema adecuado de reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales instrumento clave para el reconocimiento también de forma certificable de las cualificaciones de todos los trabajadores y trabajadoras

por tanto también medidas de cualificación para todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de larga duración que se encuentran en desempleo ahora mismo

que habiendo desarrollado toda una vida laboral se encuentran en una situación de desempleo lanbide debe proporcionar herramientas formativas para

una formación personalizada dirigida desde los servicios de orientación debe impulsar programas de formación continua que posibilite

los conocimientos a los trabajadores y trabajadoras debe hacer una apuesta decidida

decidida tanto de los centros formativos como de las empresas formación ajustada a las necesidades de esas empresas pero siempre con un compromiso de contratación por parte

una formación que de forma directa también debería de incidir en la mejora de la competitividad de las empresas y la consolidación de empleo estable formado y de calidad también un lanbide con profesionales bien formados cualificados y especializados

de actuación del servicio todo ello como decía al principio basado en el diálogo y el consenso entre fuerzas políticas agentes sociales y agentes

un consenso necesario para dar un paso firme y decidido para poder desarrollar una reforma real efectiva que haga de lanbide un instrumento útil un servicio enfocado realmente a la puesta en marcha de políticas activas de empleo un servicio vasco de empleo universal como decía antes integrados activador motor en la lucha contra el desempleo

de ayudas sociales un servicio a la altura de las necesidades de este país y sobre todo de sus trabajadores

por eso es importante que desde el arranque de esta legislatura

en esa reforma que necesita lanbide porque es obligación de las administraciones públicas en este caso del gobierno

de inserción real de orientación y formación para la búsqueda del mejor empleo adecuada a sus capacidades y que les permitan un salario digno para finalizar creo que el acuerdo

hoy de forma casi unánime muy mayoritaria en esta cámara creo que es un paso firme una buena base para afrontar desde la responsabilidad esa reforma de lanbide

handiagokoa cuando

y vemos que este gobierno tiene definida su estrategia una estrategia cimentada en principios sólidos eficiencia equilibrio territorial participación y consenso transparencia señora guanche el gobierno no se olvida de estos

al avanzar en este reto nos enfrentaremos con seguridad a amenazas

el déficit demográfico y el envejecimiento de nuestra población

y otras amenazas nos irán apareciendo en este avance aun así también contaremos con claras oportunidades que debemos aprovechar el relevo generacional el potencial de aportación laboral de las mujeres de las personas de más edad y de los y las jóvenes la mayor aportación de las personas trabajadores dentro de las empresas en sus empresas y la gestión más transparente de estas

sus nuevos ámbitos de oportunidad la atracción de inversión productiva exterior la atracción de talento los sistemas de educación formación y empleo en conexión con mayor anticipación y mejor orientación a las necesidades del tejido productivo este gobierno ya tiene definidos los seis

en la estrategia vasca de empleo dos mil veinte activación cualificación y competencia generación de oportunidades igualdad de oportunidades empleo de calidad

un sistema vasco de empleo eficaz y eficiente que ofrezca servicios de valor este gobierno va a mejorar el actual servicio vasco de empleo de forma que integre todas las políticas que indicen en el empleo y ofrezca servicios más orientados

y empresas para proceder a la reforma y modernización del servicio público de empleo el gobierno dotará a lanbide de herramientas que le permitan reforzar las funciones de orientación

de empleo a colectivos con mayores dificultades y al diseño de itinerarios individualizados de inserción laboral en esta reordenación se abordará la colaboración con los servicios sociales para la evaluación y gestión de las prestaciones económica de carácter social con el objetivo de optimizar la activación e integración laboral de las personas perceptoras evitando su cronificación en situaciones de marginación social

ejes de nuestro acuerdo de gobierno y este gobierno va a mejorar lanbide reforzándolo

desde que se registraron las iniciativas que hoy debatimos así como las correspondientes enmiendas hasta el momento hasta este momento ha habido a mi entender cuestiones a destacar además de los contactos mantenidos por los grupos parlamentarios intensos contactos la comparecencia de la consejera en comisión el pasado día dieciocho para presentar las líneas generales de actuación de su departamento para esta legislatura

de actuación destacó entre otros el capítulo destinado a lanbide como ustedes ya han comentado me gustaría utilizar planteamientos desarrollados por la consejera

determinación de margen de mejora consenso en segundo lugar en este planteamiento de reforma y modernización y participación de todos y todas

los factores negativos que se le atribuyen a lanbide en su gestión factores que yo tampoco tengo duda han influido en su acción pero que se deben en gran medida en gran medida a que el servicio se puso en marcha en el momento más crítico de

una herramienta muy joven como aquí se ha recordado en unas circunstancias muy adversas esto es objetivo y no es justificación hueca aun así podemos constatar que el propio estado español califica a lanbide como el mejor servicio de empleo del estado

o cuando observamos los índices de intermediación vemos que estamos muy por encima de la media de las comunidades autónomas sí aquí también se ha dicho con un tres coma veintisiete por ciento

es cierto señora garrido también lejos del cinco por ciento que nos habíamos marcado como objetivo sí es cierto pero también es cierto que la tendencia

en este índice es muy positiva son datos son datos señora

no es autocomplacencia son datos tampoco tengo ninguna duda

y a la cambiante situación de los últimos años todo esto demostrado por las auditorías realizadas

pero no es suficiente efectivamente no es suficiente para nosotros no es suficiente para este gobierno esto no es suficiente para la consejera esto no es suficiente

ser referente europeo en el fomento del empleo de calidad ese es nuestro margen de mejora asumir responsabilidades señora garrido

hacer este análisis determinar ese margen de mejora

y empezar a trabajar a partir de ese momento es importante

la segunda cuestión que quería trasladar consenso garantizar un alto de nivel de consenso en la reforma y modernización de lanbide es fundamental

y económicos aquí se ha desarrollado esa idea también y para ello es esencial la imagen que hoy damos ante esta cámara o desde esta cámara mejor dicho

en este acuerdo transaccional es de inicio a mi juicio una buena noticia para lanbide es una pena que no sean cinco pero

es una buena noticia y es una buena noticia para toda la ciudadanía

al consenso tercera cuestión que les quería trasladar participación además del impulso del impulso de inicio necesitamos que esta modernización de lanbide se nutra de contenidos

que nos ayuden a todavía a impulsar más a avanzar más señora garrido por supuesto que no es la última vez que vamos a debatir sobre lanbide sería malo que fuese la última vez que vayamos a debatir sobre lanbide eso es participación eso es participación

no sobra nadie somos necesarios todos y todas no se excluya el gobierno vasco ya está en marcha la propia consejera nos informaba que ya se estaban manteniendo reuniones y contactos con los diversos agentes de la empresa de la parte social y de las organizaciones laborales

buen acuerdo de inicio creo que también hay que reconocer hay que reconocer como se ha hecho aquí también el trabajo de los profesionales de lanbide

yo lo reconozco reconozco la dedicación la capacidad de empatía la capacidad de ponerse o de intentar entender los argumentos

aportamos todos y todas tenemos que aportar en este proceso con lo cual sirva de aquí ese detalle hacia

esa participación en esta cámara también me gustaría invitar al partido popular a la señora garrido a sumarse

con su voto es un texto que objetivamente señora garrido supera claramente su texto

mejora consenso participación esto es lo firmado esto es lo que este gobierno va a cumplir eskerrik asko

cumpla con los compromisos como lo hizo con los compromisos

el señor aburto hace cuatro años en su primera comparecencia donde nos esgrimía

que esta consejera la nueva consejera ha tenido que volverlas a reiterar

en su primera comparecencia pues desde luego no tenemos mucha credibilidad en este gobierno ni mucha fe yo sigo lamentando que el lehendakari el lehendakari de un gobierno que está esgrimiendo continuamente

que la prioridad de este gobierno es el empleo y las personas pues en un debate que tiene que ver con el empleo la principal preocupación de los ciudadanos vascos todavía tendrá cosas más importantes que hacer pero no haya aparecido en este

desde el grupo popular desde luego creemos que no estamos hablando de simples carencias

en el dos mil once era una verdadera oportunidad

ayudas sociales a la empleabilidad y ahí este gobierno ha fracasado por lo tanto

me sorprende que diga usted que sigue con el problema que ha de ser útil lanbide

que siendo socio de gobierno del gobierno del señor urkullu y compartiendo responsabilidades de gobierno el partido nacionalista y el partido socialista me hable usted

la señora artolazabal se encargó y a preguntas de esta parlamentaria

dijo claramente ha trasladado que hemos anunciado una reforma integral de lanbide

de actualización y modernización de lanbide hombre choca que esto lo diga la consejera choca en primer lugar la discrepancia

o a añadir al tipo de reforma que tenemos que hacer pero desde luego choca como digo y lo he dicho en mi primera intervención porque cuando el consejero

que decía que las empresas pasan de lanbide

de una simple reforma de lanbide no estamos hablando de retoques de parches que desde luego intenten tapar su inacción durante estos cuatro años

después de seis años de andadura de lanbide que no estamos hablando de un organismo

y después de que usted nos repitiera en su comparecencia

pero usted para traer aquí y su gobierno el gobierno

está esas propuestas eso evidencia y constata claramente que ustedes no han hecho nada durante cuatro años que se han pasado cuatro años en blanco

fundamental para ponerlo al servicio de los ciudadanos vascos y han perdido el tiempo

todos los ciudadanos vascos con el gobierno de ustedes durante estos cuatro años

un acuerdo que intenta poner parches un acuerdo que no pone realmente los deberes que hay que poner a este gobierno y desde luego un acuerdo que no habla de una reforma en profundidad de lanbide un acuerdo que se dilata en el tiempo cuando

que su predecesor en el cargo en la última comparecencia nos anunciaba que había un estudio que había un informe de expertos dónde está ese informe de expertos que podía ser un punto de partida es que el acuerdo que han alcanzado ustedes en esta cámara

y creo sinceramente que los ciudadanos vascos las ciudadanas vascas hemos ya perdido mucho tiempo con este gobierno en poner medidas efectivas para que lanbide

encomendados combatiera el fraude las situaciones abusivas ponga realmente la empleabilidad

vascos conecte las prestaciones económicas con el empleo y en definitiva que haga un sistema justo sostenible y solidario

antes no me he dado cuenta de comentar señora garrido que sin que sirva de precedente estamos de acuerdo en alguna de las cosas que ha dicho

nosotras hemos entendido que tal vez hemos entendido mal que usted plantea que el contacto o la participación de los agentes no es importante para nosotras es esencial en este sentido entendemos que en lugar de cuatro meses

puede introducir la posibilidad de más y mejor participación

sea un error pero en nuestra opinión la participación precisa de tiempo en todo caso señora garrido creo que en mi exposición ha estado bastante claro que las carencias que contemplo son de fondo y de calado no son meras

nos parece interesante que desde luego la principal preocupación de este gobierno sea el empleo

son las personas y sus necesidades en cualquiera de los casos felicito

entiendo que los partidos que soportan al gobierno son los que tienen parte de responsabilidad en esto sé que para que llegar a este acuerdo todas hemos dejado pelos en la gatera

siempre se agradece pero que nadie piense o que nadie de por supuesto que esto supone una renuncia al fondo de lo que entendemos que hay que transformar y que es urgente transformar entendemos que este acuerdo es un punto de partida urgente y necesario para la ciudadanía vasca

creo que hay cosas en las que no coincidimos que reconozca usted un margen de mejora dándose golpecitos en el hombro suena poco creíble

necesidades necesita que su margen de mejora se reconozca sin titubeos

ya lo comentaba el otro día en la comparecencia con la consejera y lo repito hoy hacer eso es andar justito

y para acabar las once parlamentarias de elkarrekin podemos hemos venido a trabajar para la ciudadanía no hemos venido

o a ganar un partido hemos venido a buscar que la ciudadanía vasca cuente

de calidad y cuente con que sus derechos están reconocidos y garantizados y desde aquí seguimos tendiendo la mano a cuantos acuerdos

eskerrik asko presidente andrea mire señora garrido creo que

de calificación usted se ha tirado prácticamente

calificando lo que ha sido lanbide hágame un favor mire al futuro

para avanzar no para mirar al pasado no para repetir los errores sino para buscar soluciones que permitan mejorar como decía

hemos reconocido que no funciona de manera adecuada

la labor de todas las personas de los trabajadores y trabajadoras de lanbide que se están dejando la piel adelante ese servicio y por favor no generalice el fraude usted ha venido con esta proposición no de ley supuestamente a hablar del servicio vasco de empleo y se ha descubierto usted sola gran parte de su discurso ha sido sobre la rgi

y no lo ponga a la par el servicio vasco de empleo se lo he dicho en mi primera intervención

de empleabilidad de fomento del empleo no un mero gestor de una ayuda social y usted sola se ha descubierto pero permítame una cosa sobre todo no vayan de adalides de generación del empleo cuando el gobierno del partido popular es la principal guillotina a través de su reforma laboral de la cercenación de los derechos de millónes de trabajadores y trabajadoras de este país

si quiere sacar pecho lo haga pero por favor lo haga de manera mucho más modesta

que nos ayuden que colaboren que hagan este camino con los diferentes grupos parlamentarios que nos hemos puesto de acuerdo para avanzar no para calificar como le decía

anteriormente no es momento de seguir continuamente haciendo balance de lo que ha pasado hace cuatro años porque todos lo hemos hecho en nuestra primera intervención

para ponernos de acuerdo y reconocer que el servicio vasco de empleo no es eficaz no es eficiente ustedes como decía

a hablar de la esencia de su discurso de la demonización de los miles de vascos y vascas

absolutamente injusto decía que en fin que considera que esto es un parche pues en fin creo

que debe ser el camino que deben de ser las aportaciones que cada cual debe de hacer para que este servicio vasco de empleo sea los suficientemente eficiente le invito

nos ha dicho ni qué quiere que sea el servicio vasco de empleo lanbide

las herramientas o el camino que ustedes van a seguir para mejorar ese servicio no creo que sea un parche yo creo que este acuerdo es un gran acuerdo

fundamental una base importantísima para empezar a andar en eso que yo sí considero que es una reforma integral de lanbide

y una modernización de lanbide y la señora consejera considerará que eso no es una reforma integral de lanbide cada cual

lo que usted nunca podrá poner en duda es el compromiso

ni el partido nacionalista vasco ni por supuesto del gobierno que a través de un que a través de un pacto ha puesto de manifiesto su firme voluntad de mejorar reformar y modernizar el servicio vasco de lanbide de verdad que me da pena que ustedes hoy no se hayan sumado a este

intervención porque creo que hubiese sido muy positivo hubiese sido muy enriquecedor y porque sobre todo creo que el acuerdo que hemos alcanzado va mucho más allá incluso de lo que ustedes exponían en cualquier caso ojala que este sea un primer gran paso un primer gran acuerdo

podremos alcanzar en esta cuestión en esta materia si verdaderamente todos estamos dispuestos a trabajar desde la honestidad sinceridad y sobre todo desde la firme voluntad de mejorar un servicio que creo que es

señora garrido estoy seguro que

estoy seguro también estoy seguro

con anterioridad en muchas ocasiones y usted intenta dar una imagen de que los demás no se mueven cuando realmente

creo que es justo la imagen contraria a un compañero suyo le gusta hablar mucho del día de la marmota realmente yo escuchándole a usted

su discurso no en el debate usted estaba en el día de la marmota no voy a calificar mucho más su discurso

que lo conozco listado de adjetivos que los va cambiando de lugar listado de personas que han tenido responsabilidades

a una conclusión que es algo así como cuatro años en blanco no sabe que no es así

en un planteamiento de datos atropellados datos revueltos

pero sí es constatable que hay algunos datos y voy a dar uno muy concreto un dato muy concreto y estamos hablando de empleo

el índice de eficacia en inserción laboral aquellas personas que han pasado por lanbide

de haberles prestado lanbide ese servicio llegan a contrato laboral en dos mil trece un catorce coma siete por ciento en dos mil quince un veintiocho por ciento se ha publicado está publicado

esa es una cuestión constatable para esas personas es una cuestión constatable para esas personas lanbide es una herramienta

yo no he dicho en ningún momento volveré a revisar pero estoy seguro que aún revisándola no lo he dicho he dicho que lanbide tiene un margen de mejora que eso es lo que recogemos en nuestro acuerdo

desde la intervención en comisión de la consejera también se reconoce

además es que no lo podría decir porque sería faltar a la verdad sería faltar a lo que realmente pienso y lo que realmente

y lo que realmente se me traslada responsabilidad con el empleo este gobierno ha determinado siempre su responsabilidad con el empleo y lo decía en mi intervención anterior

mejora consenso y participación es una excelente noticia que hoy ese planteamiento también esté recogido

el objetivo de este gobierno el objetivo de esta cámara creo que es compartido

creo que es compartido y ese primer paso es esencial

impulso es esencial a nuestro entender realmente es una pena esa imagen de cuatro menos uno sería ideal una imagen de cinco eskerrik asko

aldekoa sesenta y seis contra beraz jatorrizko testua

presidenta hasta antes de ayer y durante medio siglo ciudadanos vascos que decidieron organizarse para asesinar a otros ciudadanos vascos o de otros lugares de españa

ciudadanos vascos y de otros lugares de españa que respondieron a esa agresión desde la ilegalidad considerando a los primeros enemigos

hasta antes de ayer también y durante medio siglo hubo vascos que sufrieron a unos o a otros

que vivieron alejados de esa realidad que la conocían por los telediarios o por las portadas de los periódicos hoy no hay ya vascos amenazados en su vida por tener una opinión

que siguen reclamando memoria que siguen reclamando la verdad que siguen reclamando que se elimine de cualquier imaginario que alguna vez pudo haber alguna razón una sola

la amenaza el miedo vivido en carne propia ninguna razón política ni ninguna razón de estado y que el conjunto de la sociedad

quienes consintieron quienes aplaudieron o incluso quienes ni siquiera se sintieron concernidos así lo entiendan porque solo esa deslegitimación radical

y vacunarnos contra cualquier tentación futura de volver a usar la violencia esa es la convicción con la que los socialistas queremos abrir un foro que trabaje desde la discreción desde el rigor y los principios éticos irrenunciables para que quienes representamos a los ciudadanos y ciudadanas seamos capaces de alcanzar acuerdos sobre cuestiones pendientes

de compartirlo con el resto de españa y con su gobierno porque nos parece imprescindible que el gobierno de españa como ya hizo en algunos momentos del pasado se implique

de quienes han sufrido por eso queremos que esté el partido popular señor sémper nos gustaría mucho que ustedes estuvieran porque hemos compartido con ustedes esa misma trinchera de resistencia ante el acoso y el terror defendiendo nuestras posiciones políticas aunque se quisiera eliminar nuestras papeletas electorales

más allá de algunas declaraciones que no compartimos y de actitudes políticas de las que discrepamos respiramos la misma libertad el día que hace cinco años eta dijo que no mataría más y compartimos esa nueva vida

con profesores universitarios con jueces con periodistas con empresarios con funcionarios de prisiones

tampoco concebimos la convivencia futura que se construya prescindiendo de la deslegitimación radical del terror el del pasado

de cualquier explicación que pudiera dar sentido a lo ocurrido porque memoria de las víctimas sin deslegitimación de los victimarios sería pura y simplemente un fraude y un fraude a las víctimas del terrorismo pero también a los resistentes y a la sociedad civil que ha luchado contra el terrorismo y si en esta cámara todos sin excepción asumimos esta bases creemos que se nos abre una oportunidad

trabajar un acuerdo trasversal entre los representantes de los vascos porque el terrorismo padecido

así como sus posibles salidas ha sido un problema entre vascos entre vascos que querían vivir y pensar como quisieran y vascos que no se lo querían permitir

como ya hemos señalado lo que hagamos aquí debe ser entendido y acompañado también por las instituciones del gobierno de españa

trabajemos además de sobre bases éticas desde el rigor desde el consenso y desde la discreción porque queremos recuperar confianzas y traducirlas en acuerdos es verdad que hay muchas cuestiones pendientes que van a ser ajenas a lo que digamos los representantes políticos

y ya está tardando la desaparición de esa banda es un anhelo compartido por los demócratas que nos negamos a que nadie con armas pueda pretender

ni siquiera aunque lo haga como si fuera un espectro le volvemos a exigir hoy la desaparición total y definitiva y a nosotros nos corresponden otras tareas

a las que se organizan en asociaciones y a las que no están organizadas a las cerca de trescientos familias que siguen reclamando aclarar quién mató a sus allegados sin que quienes participaron o lo supieron les estén ayudando a cerrar ese relato completo

y también a quienes sufrieron vulneraciones de sus derechos por un abuso ilegitimo de poder también nos corresponde encontrar un camino para aquellos presos que quieran romper con su pasado pero también para aquellos que aunque se niegan hacerlo acabarán cumpliendo sus condenas y cuando salgan a la calle

contra la que atentaron en su día se encontrarán que no consiguieron ningún logro político de los que quisieron imponer y que todo lo que en euskadi ha podido avanzar ha sido posible

la que nos conceden los ciudadanos en las urnas tenemos que hacer posible que entiendan su fracaso para que se puedan reinsertar en una euskadi que es justo lo contrario

una euskadi plural diversa donde cada uno nos sentimos como nos da la gana donde cada cual vota lo que quiere y donde lo que pensamos distinto los que pensamos distinto

aquello que nos une para el progreso de todos con sus defectos y con sus virtudes nosotros no pretendemos que hoy se habrá aquí un debate sobre las diferencias que podamos tener en esta materia porque sabemos que las tenemos lo que queremos es abrir esta ponencia para encontrar justo lo contrario

y por eso no voy a entrar en descalificar las enmiendas que puedan producirse por parte de otros grupos el pp nos propone un nombre para la ponencia que rescata

decir una idea de una persona de su mismo partido que no hace mucho

y convivencia como hacemos nosotros es precisamente tener en cuenta a quienes sufrieron en el pasado para construir el futuro bildu nos hablaba de añadir el término paz y para nosotros la paz era

bajar la basura pasear en bicicleta salir de vinos con los amigos llevar a sus hijos al colegio ahora se puede hacer

lo que debemos es construir un proceso de convivencia que culmine en la superación del odio del fanatismo porque quedan rescoldos pocos pero existen en ciertas zonas y ambientes de la sociedad como hemos visto no hace mucho tiempo en cuanto a elkarrekin podemos llena de contenidos la ponencia en una agenda que siempre podía ser matizada pero me felicito de que todos hayamos sido capaces de encontrar

de esta ponencia nuestro pasado tiene mucho dolor por desgracia y tiene muchas cosas positivas entre estas la capacidad que llegamos a tener en otros momentos con el terror azotando la vida de tanta gente para llegar a acuerdos transversales que desde la legalidad la ética y la complicidad de las víctimas

esa es la referencia que nosotros al menos tenemos para ponernos a trabajar en esta ponencia

en las urnas y motivos teníamos para poder haberlo hecho las que tomemos en el futuro tampoco van a responder a ningún cálculo electoral solo a una convicción ética de rechazo

un rechazo expreso a quienes usaron la excusa de eta para abusar de su poder y también con un compromiso el de la memoria verdad justicia y reparación de las víctimas sin equidistancias ni paralelismos pero también sin exclusiones de ningún tipo y con una voluntad clara que no dejemos en herencia un país desmemoriado porque ese olvido sería una nueva injusticia para todos ellos y que lo que hagamos sirva para impedir que en este país

al diferente por eso solicitamos a los grupos de la cámara y vuelvo a felicitarme por el amplio no total por desgracia señor sémper pero muy amplio acuerdo

ponencia que creo que es muy importante para esta sociedad eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria iturrate jauna zurea da hitza

oroimen kritikoa onartu llevamos años enfrentando el reto de construir la memoria y la convivencia en euskadi

años elaborando políticas para enfrentar sus consecuencias para reconocer y reparar a las víctimas en este parlamento hemos avanzado mucho

presididas entonces por el que hoy es lehendakari hemos contado con ponencias de paz y convivencia y ahora

la constitución de la ponencia de la memoria y la convivencia en la pasada legislatura

que nos convoca hoy nuevamente aglutinar a todas las sensibilidades ideológicas en torno a un debate que sigue siendo hoy tan necesario como entonces

aquel grupo de trabajo es verdad se quedó pronto cojo y tuvo un corto recorrido en este parlamento sabíamos entonces que su gestión sería complicada y difícil lo fue y ahora vemos que lo sigue siendo lo comprendo han sido muchas décadas de terrorismo violencia

y es evidente que esto ni se resuelve ni se supera de un día para otro las heridas están aún abiertas sanarlas llevará tiempo lo comprendemos pero es nuestra obligación perseverar es nuestro deber esta es también nuestra responsabilidad

o si nos desentendiéramos de este deber público queremos

queremos ir curando las heridas queremos y debemos ir curando las heridas estamos emplazados a ello tenemos que responder y contribuir a que se den los pasos necesarios y más emplazados y más pasos lógicamente

la ponencia planteada en dos mil trece era útil como instrumento para consolidar el nuevo tiempo abierto tras el anuncio del abandono de la actividad armada por parte de eta sin embargo hace cuatro años no se dieron las condiciones para facilitar un diálogo sincero y plural quisiera pensar que hoy cuatro años después

seremos capaces de asumir que este foro parlamentario es nuestro espacio natural para ese diálogo sincero plural crítico y constructivo

debemos reconocer que si nos enquistamos en actitudes del pasado si nos aferramos a la terminología que nos separa nunca seremos capaces de avanzar

la que nos ofrezca ejemplos de diálogo entendimiento y superación bizikidetza memoriaz eraikitzeak merezi du merezi du guztiok aurrerapausoak ematea

de violencia hay más pasos que dar el paso del desarme y la disolución definitiva de eta el paso del reconocimiento del daño injusto causado y se debe dar también el paso de adecuar la política penitenciaria a esta nueva realidad

iniciativas de reinserción nos corresponde pues trabajar buscar facilitar caminos de unión nuevos caminos que respetando los derechos humanos nos conduzcan a la convivencia normalizada emplazamos a dar pasos sin cálculos de oportunidad buscando el bien común de la convivencia futura pero también nos ponemos deberes a nosotros mismos mirar al futuro no nos puede hacer olvidar el pasado es preciso asumir la propia responsabilidad

injusto fue en definitiva ilegitimo el futuro de la convivencia se debe asentar sobre unos principios sólidos memoria respeto a las víctimas y defensa de todos los derechos humanos así lo vemos así lo queremos y así lo hemos querido trasladar hoy aquí con esta proposición no de ley

queremos que esta ponencia se convierta en un espacio plural para el diálogo un diálogo abierto sin vetos sin límites un diálogo sincero y responsable un diálogo asentado con firmeza sobre la base de los derechos humanos y los principios democráticos

en julio de dos mil doce este parlamento demostró capacidad para acordar una base firme una base que hoy reafirmamos una resolución que hoy leemos detenidamente nuevamente y ratificamos en su integridad

y del daño causado y la dignidad de las víctimas merecedoras todas ellas de la verdad justicia y reparación

más extenso y plural es un suelo común firme sabemos que tenemos que avanzar más que hay que ir más allá podemos hacerlo con seguridad solo es necesaria un actitud constructiva y una voluntad compartida

que las hay y son legítimas también las debemos compartir porque contamos con el foro natural para el diálogo demostremos una nueva actitud

escuchar apuntalar lo que nos une y trabajar pensando en el futuro esa es la actitud y el espíritu que nos han guiado a la hora de acordar una transacción con la mayoría de los grupos de esta cámara que sometemos a su consideración

zor dioguna nahi dugun etorkizuna eta herri honek merezi duena es un acuerdo que a pesar del esfuerzo realizado no ha podido ser unánime

presentadas por todos los grupos parlamentarios no es un acuerdo completo pero sí es un acuerdo muy amplio que acoge a la inmensa mayoría de este parlamento

de todos los grupos parlamentarios y muy especialmente el de elkarrekin podemos y el de euskal herria bildu a quienes agradezco el acuerdo alcanzado la clave para avanzar es admitir que en la ponencia se abordarán todas las propuestas presentadas por los diferentes grupos la clave para avanzar no es establecer como

aquello que a de ser el propio objetivo de la ponencia la ponencia es un espacio para dialogar y para buscar acuerdos es

el diálogo en la ponencia el trabajo compartido va a permitir identificar las claves terminológicas y de contenido que hagan posible plasmar de un modo consensuado ese acuerdo

recordar el pasado reciente para evitar caer en los mismos errores que nos impidieron avanzar asumir que nuestro deber es arriesgar movernos de nuestras posiciones para facilitar que todos caminemos juntos reiterar que tenemos una oportunidad para avanzar en una sociedad capaz de convivir en paz y en libertad y en esta tarea

y todos somos necesarios lo peor es el estancamiento y solo nos conduce al fracaso la ponencia es nuestro foro natural plural y compartido es el espacio para discrepar y para avanzar el espacio para debatir y para acordar el espacio abierto a todas y a todos el espacio en el que los presentes

y debemos a este pueblo el futuro que queremos y que este pueblo se merece eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna

hitz egin gabe egon naizela veintiocho años sin hablar ya me perdonarán

y principalmente quería hacer un homenaje a todas esas personas

siento haberme emocionado pero a veces las personas somos humanas

y creo que la política también se debe de humanizar como os decía

la definición de la ponencia de memoria y convivencia se puede resumir en que sea un espacio plural donde estemos representadas todas las fuerzas políticas

y lo que tenemos que hacer es poner sobre la mesa todas las vivencias ocurridas y todas son todas las de todas las personas que hemos sufrido

y por supuesto lo que tenemos que hacer es ser capaces de mirarnos a los ojos de escuchar a la otra persona de entender por lo que ha pasado escucharla sin juzgarla de respetar lo que ella piensa

porque las vivencias que hemos tenido son diferentes pero sobre todo lo más importante desde el respeto desde el respeto y por supuesto desde la defensa total y absoluta de los derechos humanos de todas las personas

dándonos la oportunidad de conocernos y reconocernos en el dolor y en el sufrimiento injusto

y que a veces nosotros hemos ignorado no hemos querido reconocer que la otra persona sufría incluso a veces hemos despreciado calladamente y lo que es peor a veces se ha apoyado incluso con leyes que no son ni justas ni humanas a esto tan sencillo y tan duro a la vez

a todas las víctimas sin excepción construir una memoria inclusiva deslegitimar la violencia revisar críticamente el pasado o construir una memoria democrática gu

aurre egin behar diegu todas las personas

tienen derecho a la verdad a la justicia y a la reparación pero debemos atender especialmente a aquellas que han sufrido

sufriendo el desamparo institucional o legal y aún hoy siguen sufriendo me gustaría leerles un

del que tengo la suerte de pertenecer todas las víctimas sean del signo que sean tienen el mismo derecho

la verdad la memoria el reconocimiento y a la reparación la diferencia de trato y consideración entre unas y otras víctimas

aplicación de la justicia y de la ejecución penitenciaria la ausencia de reconocimiento institucional y la negación de esos derechos para algunas víctimas incumplen el valor de justicia e igualdad en derechos

quiero insistir en el término verdad en el concepto verdad en el principio verdad

que hemos padecido el terrorismo de estado personas que han sufrido por la extrema derecha todos esos casos están sin esclarecer también los abusos policiales

horregatik iruditzen zait que esta legislatura y esta cámara debe la ponencia de memoria y convivencia debe servir para poner en marcha todos los mecanismos suficientes y necesarios

para que estas víctimas también accedan a su derecho a la verdad a la justicia y a la reparación por tanto yo considero que sería importante

abrir los archivos policiales de la guardia civil los de la policía nacional

y desclasificar los documentos secretos todo eso contribuiría a esclarecer muchos de estos casos

que personas que han ejercido la violencia rectificaran y colaborasen con la justicia irizten gara ponentzia honetara

las verdad es que cuando abordamos estas cuestiones en esta cámara hoy

de sentimientos de vivencias de nuestra manera de haber conocido la política aquí en el país vasco

de quienes han sufrido han padecido el dolor de las víctimas en un día que casualmente ha coincidido con el aniversario

que para el partido popular sigue siendo muy importante de lo que él decía de cómo era del mensaje que quería dar y cuando se recuerde y se homenajea a una persona que fue injustamente

o para que se callara o para que hubiera miedo a decir las cosas

de silencio sobre el conjunto de la sociedad vasca pues a mí me viene efectivamente la reflexión de qué significó su vida y por qué eligió ser libre porque a gregorio ordoñez como a todos los demás

nadie nos obligó a meternos en política nos metimos en política porque queríamos luchar por la libertad y ya sabíamos que teníamos una alternativa oiga no se meta usted en eso no le va a pasar nada porque durante mucho tiempo en el país vasco efectivamente si no te metías en eso no te pasaba nada

e incluso iba contando uno fuera aquí en euskadi no pasa nada

a unos a los que se meten en política o los que luchan por una idea determinada y están en un lado que no le gusta a una organización terrorista o a otra organización terrorista porque hemos tenido varias organizaciones terroristas en euskadi y durante mucho tiempo ese fue el problema gregorio no vio el final de eta nosotros vamos a ver

y nosotros vamos a ver el final del terrorismo en euskadi él no lo vio pero él contribuyó decisivamente

porque dedicó su vida y su esfuerzo político precisamente a deslegitimar

y dedicaba sus mejores esfuerzos a con palabras muy duras descalificar a eta

pero les miró a la cara y fue muy duro con ellos e inició un camino de deslegitimación que fue ganando cada vez más espacio en la sociedad vasca en el conjunto de la sociedad española y movilizando

a una organización terrorista que siempre contó con apoyo político y con apoyo social muy importante en euskadi

por qué ha durado tantas décadas eta duro porque tenía apoyo eta duro porque tenía apoyo político tenía apoyo social

eta duro porque incluso aquellos muchos que decían que no estaba bien matar

mate o no mate ejerza o no ejerza la violencia qué es

y por qué duro tanto porque aquí ha habido un apoyo social y político al terrorismo y yo creo que es verdad que hace falta una ponencia en el parlamento vasco no es nueva ya hubo esta misma ponencia en la legislatura pasada

la legislatura pasada yo no le voy a decir nada al señor pastor porque es verdad hemos compartido muchas cosas juntos

con los demás grupos pero particularmente con el partido socialista entraron y tuvieron que salir de la ponencia qué hay distinto esta vez no hay nada distinto

esa es la única diferencia que hay respecto de lo que pasaba la legislatura pasada pero qué es específico en euskadi

el de quienes siguen comprendiendo legitimando y aplaudiendo el terrorismo

vienen a euskadi y son recibidos por homenajes que les realizan jóvenes adolescentes de quince años en los institutos vascos cómo es posible eso

nuestra obligación si queremos construir un futuro es trabajar para que mañana

cuando les cuenten que hubo vascos que empuñaron las pistolas para matar a otros vascos porque pensaban distinto y porque querían imponer un proyecto

yo quiero que esos vascos del futuro piensen que eso era una vergüenza y que lo rechacen radicalmente

que les parezca que eta es una parte de la historia que hizo una determinada aportación encabezaba un movimiento político legítimo por medios erróneos yo no quiero que piensen eso y eso es lo que todavía se piensa y eso es lo que todavía está en la calle y eso es lo que hace que para constituir esta ponencia y que entre quien se quiere que entre pues hay que prescindir de algunas cosas hay que prescindir de una exigencia ética mínima

no puede ser el objetivo una ponencia ese camino ya lo habíamos recorrido supone sin duda

en todo lo que había avanzado también esta cámara en lo que habíamos considerado que era la base ética en la que nosotros nos íbamos a relacionar ahora es una exigencia de la que se le alivia

a la izquierda abertzale al grupo de los parlamentarios que no quieren condenar

y que no quieren reconocer tampoco que el relato necesario del futuro de euskadi es un relato en que efectivamente hay vencedores y hay vencidos

en el que gana lo que tenemos de bueno en el que gana nuestra posibilidad de convivir entre diferentes en el que gana una euskadi que se vive con distintas identidades y no se puede excluir al otro

y es un relato donde sí hay alguno que está derrotado que esta fuera de la historia que son todos aquellos que quisieron imponer su ley a los demás por medio de la violencia ese es el relato necesario para construir el futuro de euskadi al que nosotros queremos hacer y me apena

no poder participar en un esfuerzo común y que no se haya querido que efectivamente la ponencia el trabajo y el esfuerzo que tenemos que realizar juntos sea precisamente ese que da respuesta a una realidad que todavía no se ha borrado de euskadi porque las consecuencias del terrorismo en euskadi todavía no han desaparecido y están ahí

se sientan en esta cámara me duele de verdad que no se haya querido ver esto pero tengo que explicar

presente en esa ponencia mientras no se den algunos pasos necesarios primero un objetivo claro

un segundo compromiso claro que la gente que se sienta ahí a trabajar con nosotros en ese objetivo tiene que haber aceptado unas condiciones éticas mínimas

porque lo contrario es hacer otro ejercicio quizás aparcar ese debate incomodo en una sede parlamentaria menos

o quizás qué ofrecer una pista de aterrizaje a quién para qué

claro es muy difícil decir que se está en condiciones de acordar y compartir una visión de país

determinante que hacer porque todavía es incapaz de decir que matar estuvo mal que jamás tuvo justificación

es muy difícil pero yo creo que nos estábamos jugando nosotros algo que es más importante y que es más trascendente para todos y que es el marco

y en que las víctimas del terrorismo y de todos los terrorismos sí son diferentes

hay un profundo significado político en ellas y el significado político de las víctimas del terrorismo no depende de lo que ellas pensaran

depende de quién los mató y por qué lo mataron porque los mataron en nombre de un proyecto político que se quería imponer

y de palabra me gustaría que la ponencia que se constituye hoy tuviera ese objetivo de deslegitimar y de que ya no haya jóvenes que quieran hacer homenajes a asesinos terroristas cuando terminan sus condenas y vuelven a su casa y que en cambio sintieran y que pudiéramos crear entonces un ambiente en el que favoreciéramos que todos aquellos que estuvieron vinculados a la actividad terrorista directamente o a través de su apoyo

puedan de verdad colaborar en el esclarecimiento de los asesinatos que decía el señor pastor que todavía no han sido esclarecidos puedan de verdad iniciar un camino para volver otra vez al seno de la democracia y de las ideas éticas que hemos de compartir pero mientras estemos dando facilidades o ahorrando presupuestos morales o no identificando con claridad

parlamentario popular y esta es la soledad en la que nos hayamos que no es nueva para nosotros

y que hizo que dejara de matar y es el discurso que tiene que vacunar a la sociedad vasca de que en el futuro pueda repetirse lo que hemos vivido muchas gracias eskerrik asko alonso jauna

esperientzia horretatik hurbilduko delako kontzeptu honengana me temo que todavía habrá una divergencia mucho más grande con un término en este caso propuesto por el partido popular que es el de libertad los proponentes del término

a ella por sus intereses políticos particulares siguen negando

impidiendo que decida libremente su futuro porque prefiere imponer su proyecto político dentro de este marco no entendemos cómo interpreta

quien lo conculca quien lo niega continuamente pero más allá del término

la enmienda del partido popular al ver que incorporaba el texto que había sido propuesto por arantza quiroga sin embargo inmediatamente verificamos y ahora de nuevo certificamos que no incorpora la actitud o el talante

mientras sigan dándose vulneraciones de derechos humanos y mientras haya peligros

mientras no podamos garantizar que no se vuelva a producir hechos de violencia no estaremos en un escenario de paz definitiva tenemos trabajo

sin duda hay que enfrentar un escenario de desarme de eta de retirada de cuerpos de seguridad del estado hay que intensificar la reparación de todas las víctimas sobre todo

y de reparación pero a día de hoy tal vez el elemento que más nos dificulta

es la situación derivada de esa cruel política penitenciaria la situación extrema de presos enfermos que nos hacen un llamamiento

los cientos de familiares que se echan a la carretera cada fin de semana para ejercer su derecho a la vida familiar que es una verdadera espada de damocles permanente una ruleta rusa que presagia siempre la desgracia el riesgo de que más personas sean enviadas a prisión por su política social o profesional en procesos judiciales igualmente políticos es una lacra continua ahí hay precisamente que invertir estoy de acuerdo con el señor urkullu con el señor lehendakari cuando recientemente

vaticano la necesidad de insistir en los esfuerzos en pro de la consecución

justa duradera y definitiva parece contradictorio que en ese esfuerzo

reflejo en el nombre de esta ponencia tal vez ahora se cambiará también la denominación de la secretaría de paz y convivencia para tener una conexión o una similitud con el nombre que ahora le estamos dando a esta ponencia parlamentaria creo que es difícil desterrar

de esta ponencia porque somos animales de costumbres venimos de llamarle así y seguiremos espero llamándolo de esa manera o calificándola por ese término

y hoy hacemos una apelación a la altura de miras más allá de una formulación concreta más allá de palabras entiendo que este parlamento se dispone a dar pasos tendremos que labrar espacios

espacios de empatía y eh bildu estará en ello no queremos anclarnos o atenazarnos a un texto si lo que hay realmente es voluntad en el contexto que nadie ponga trabas peros o pretextos para que de una vez por todas avancemos no por lo menos por parte de los que

la sociedad las víctimas quienes a día de hoy siguen sufriendo vulneraciones de derechos humanos no solo nos lo exigen sino que además nos lo van a agradecer

yo me quiero quedar con la segunda parte de su intervención y me ha preocupado mucho la primera porque la primera parte se ha dedicado usted más a ahondar en las diferencias que en la búsqueda de consenso y yo sigo diciendo es lo que tenemos hoy ya no se mata a nadie en este país por pensar diferente

ya nadie tiene que evitar determinadas zonas del país porque se siente amenazado ya no se mata a nadie porque quien causaba

de la disolución definitiva y no hagamos comparaciones que no son exactas yo también critico vulneraciones de derechos que se puedan producir pero eso no es equiparable a quitarle la vida a un ser humano

porque era un ciudadano que pensaba distinto o porque pasaba por allí y eta decidió que era un lugar estratégico donde se podía atentar

que empecemos esta ponencia y a los pocos meses nos encontremos en una situación parecida a la que nos encontramos en la anterior legislatura porque creo que hay mimbres suficientes

esa violencia directa y esos asesinatos de compañeros nuestros de vecinos y de amigos hemos hecho la reflexión necesaria para poder compartir con todos también con ustedes

sé que cada uno tiene su propia memoria lógicamente

acabemos en la desmemoria ese es el riesgo más importante que tiene esta sociedad porque esta sociedad da por hecho que hemos cambiado de etapa que hemos cambiado de ciclo

no tiene ya preocupaciones por la violencia en este país piensa que ya estamos en la situación de paz

muy rápidamente el peligro es que la quiere pasar sin haberla leído entera y si perdemos la memoria de lo que ha pasado cada uno tiene su propio relato es verdad pero tenemos que mantenerlo fresco en la cabeza de nuestros hijos también lo que ha sido la memoria del horror que ha vivido este país tendremos el riesgo de volver a caer en una situación parecida mire señor alonso yo no voy a decir nada respecto a su intervención

usted le ha puesto más dramatización pero yo he hablado de deslegitimación del terrorismo les he dicho a estos señores que no basta solo con rechazar

políticamente la violencia si queremos que no se vuelva a repetir y nosotros hemos hablado de las víctimas del terrorismo y de otras víctimas que evidentemente

reconocidas con la señora zabala en su asociación está

comparte con usted le mató eta y todavía a día de hoy no sabe quien fue está en la misma asociación

muy parecida hay múltiples realidades personales a las que hay que atender con todo el cariño porque todas se merecen la memoria la justicia y la reparación pero yo no quiero hacer equiparaciones

de unas víctimas en contra de otras ese es el esfuerzo con el que nosotros vamos a esta ponencia y no le quepa duda de que si no vemos mimbres suficientes también lo haremos saber y lo haremos notorio

para que este tema salga adelante y salga bien y eso hay que hacerlo con rigor y con discreción como cuando idoia mendia ahí sentada puso en marcha el decreto de reparación de víctimas de otras violencias

como ahora hemos hecho para poner en marcha la ley

desgraciadamente con la amenaza de recurso por parte del gobierno de españa pero que lo hemos querido hacer con toda la seguridad jurídica del mundo porque entendemos que es de justicia

cerrando podemos empezar a hablar de ese nuevo día del nuevo día del mañana pero todos tenemos que dejar algún pelo en la gatera no la dignidad

para que esto sea posible eskerrik asko pastor jauna

es cierto todo lo que ha contado a sucedido y ha sucedido así y todo ese dolor que usted ha relatado se ha vivido en este país como también el que nos ha trasladado la señora zabala

sucedido y no debemos olvidarlo pero le ha faltado decir que ya no estamos en esa situación afortunadamente que gracias a la combinación de diferentes acciones políticas policiales y la respuesta

no estamos en esa situación y debemos debemos buscar avanzar hacia donde tenemos que caminar

el profesor reyes mate que es un experto en la materia de convivencia de memoria

que la memoria es necesaria es fundamental para construir la convivencia

para avanzar la memoria como palanca de avanza como palanca de cambio como palanca de continuar

si utilizamos la memoria como algo que nos paralice que nos mantenga continuamente mirando al pasado y sujetándonos en el avance no estaremos aplicando correctamente ni estaremos aplicando políticas

convivencia en este país y acabaremos cómo no convirtiéndonos en estatuas de sal porque

por mucho que se intente sembrar la duda una duda hiriente los principios están claros para nosotros están claros están recogidos en la resolución de la ponencia paz y convivencia de la novena legislatura que firmamos con ustedes lo hemos dicho

y lo hemos votado en este parlamento en dos ocasiones en la décima legislatura y hoy

lo he reafirmado por lo tanto no juguemos a eso el problema es que ustedes cambian el orden de los factores y en este caso

un acuerdo para poder dialogar cuando es precisamente al revés el diálogo para poder acordar es lo que estamos planteando en esta ponencia dialogar

acordar previamente para poder dialogar porque si fuese así como usted dice si un grupo parlamentario de esta cámara estuviese inhabilitado para hablar para dialogar sobre determinados temas

formar parte de la ponencia de paz y convivencia o de memoria y convivencia en este caso si no

unos mínimos éticos debería estarlo para todo o qué sentido tiene no dialogar con un grupo parlamentario si no admite determinado

para hablar de convivencia y sí para hablar en la ponencia de autogobierno sobre el marco jurídico que va a articular esa convivencia o es que no están en el mismo plano

no tiene sentido mire yo podría calificar esa actitud pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque lo que he dicho en mi primera intervención lo he dicho porque lo creemos porque queremos avanzar y porque queremos contar con ustedes para avanzar queremos que ustedes estén en la ponencia que ustedes dialoguen y trasladen a la ponencia todo lo que piensan

nosotros estaremos a su lado para apoyar que ustedes puedan defender con beligerancia sus ideas estaremos para eso como hemos estado defendiendo su derecho a ejercer la política durante tantos años

y vamos a defender su derecho pero no vamos a paralizar ni vamos a permitir que la ponencia esté secuestrada

behin eta berriro pentsatzen eta esaten ez diren gauzak cosas que se piensan y no se dicen yo durante años

de los treinta y tres años que falta mi hermano veintiocho años sin hablar veintiocho

barne gatazka bat ikaragarria y una de mis principales confusiones era que yo era creyente yo creía en dios con quince años mi hermano desapareció

difícil pensar y tener dudas de si vas a volver a poder amar yo con quince años mi principal problema era

después de todo el sufrimiento que había padecido afortunadamente soy consciente de que soy capaz de amar y afortunadamente

de dos hijos maravillosos y afortunadamente cada vez que les meto en la cama repito una frase que me recuerda siempre a mi hermano y siempre les digo lo mismo

mi hijo se llama hisham lucas y tiene un nombre que tiene un significado y un sentido

era realmente generoso y su nombre me recuerda mucho a él era mi abuelo que era pastor pastor de de ese queso tan rico

pues ese nombre tiene un significado muy especial y ese nombre es un nombre

que denota amor mis hijos cuando me oyen hablar en la tele me dicen ama no nos gusta cuando hablas del tío joxi te pones seria te pones triste es cierto la transmisión del dolor

yo lo único que quisiera en este momento de réplica es recordar un par de frases

dignas de reflexión y es que cada dolor se lleva de nosotros un pedazo de vida destrozada

se va un suspiro tras cada suspiro una esperanza con la esperanza la ilusión se aleja

y a seguir confiando en que se podrán crear leyes e instituciones

que se repita el terrible pasado vivido

podamos afirmar que la sociedad vasca tiene una más profunda conciencia de derechos humanos que nuestra euskadi plural y diversa convive de forma democrática con una memoria autocrítica

y en mejorar y en proteger a esas personas que son las que hoy en día padecen todavía unos sufrimientos injustos

y aquí insistiría en esa proposición no de ley de transferencia de la política penitenciaria que hemos presentado en esta cámara y que también se ha presentado en esta cámara en el congreso de los diputados en madrid

que una política penitenciaria mucho más humanitaria permitiría también avanzar en esta ponencia de memoria y convivencia y por último me gustaría recordar una frase muy importante que también sirve de reflexión

se trata de una frase de martin luther king y es una frase que yo suelo repetir mucho

creo profundamente que la justicia es indivisible que la injusticia producida en cualquier parte amenaza a la justicia en el mundo

en otras la conveniencia pregunta es político es popular pero la conciencia debe preguntarse es correcto

en un lugar que no es ni seguro ni político ni popular estoy convencida de que todas reconocemos que existen cosas en nuestra sociedad algunas cosas en nuestro mundo a las cuales nunca deberíamos de adaptarnos y con esta frase y esta reflexión

a formar parte de la ponencia eskerrik asko

muchas gracias quería comenzar diciéndole algo y aprovechando que estoy en la tribuna a la señora zabala

se lo quería decir bueno ella ya lo sabe pero pero también

de la intervención que ella ha hecho con tanto corazón de una manera tan personal y

somos políticos fríos miramos las cosas con objetividad pero hace falta un poco corazón

víctima del terrorismo y no solamente eso sino que cuando lo mataron

esta es la idea terrible cuando el asesinado cuya muerte se justifica se cree necesaria en nombre de otra causa y esa profunda legitimidad que tú haces adquiere el terror que es para mí lo que hace diferentes

ni en la necesidad de comprensión de apoyo de cariño pero sí de una manera muy profundamente política a las víctimas a las víctimas de los distintos terrorismos y también a la propia existencia del terrorismo y por tanto al fenómeno al que nosotros nos tenemos

su intervención si usted ha dicho las cosas que hemos compartido también el señor iturrate por dios si siempre hemos estado en el mismo lado defendiendo los mismos los mismos valores

ningún reproche ético en ese sentido a sus formaciones a ustedes mismos pero que hay gente que no acepta las reglas morales mínimas y ha habido también un discurso francamente inquietante por parte del señor arzuaga el problema señor arzuaga es que ya cada vez se da menos miedo

antes daba mucho miedo ahora da cada vez menos miedo que actitudes saboteadoras de la paz

tener que qué tenemos que hacer para que la paz sea estable duradera etcétera qué pasa que si no hacemos eso la paz no es duradera qué es lo que se quiere decir a esta cámara

ese es el lenguaje del futuro esto no tiene marcha atrás

ni tenemos ninguna factura pendiente ninguna cuenta pendiente no tenemos ninguna

y además como le digo cada vez se da menos miedo porque va pasando el tiempo

cada vez menos por tanto yo que quiero mirar al futuro quisiera que ustedes que van a estar en esa ponencia en la que

es decir aquí vamos a hablar del desarme de eta condicionado que ya la va desarmando por cierto la guardia civil muy bien

de las fuerzas y cuerpos de seguridad las condiciones de sus presos etcétera etcétera esto es lo que se ofrece para esa ponencia yo creo que nosotros necesitamos una ponencia que haga una cosa diferente en el parlamento vasco y espero que el señor pastor que va a estar

va a durar allí sepa también

que no se pliegue a convertir el parlamento vasco en un lugar donde se discute eso y se ponen condiciones para que eta haga lo que tiene que hacer que es entregar sus armas y disolverse desaparecer y pedir perdón al conjunto

de la sociedad vasca sí que esto es lo que hay y esta es nuestra posición señor lehendakari y nuestra disposición al margen de que la configuración de la ponencia su propio objetivo que aquí nos ha explicitado porque aquí se dice que se hace camino al andar pero no se dice a dónde se quiere llegar nosotros queremos llegar a un lugar muy concreto bueno pues como están las cosas nosotros no vamos a poder estar ahí pero nosotros estamos aquí y nosotros vamos a seguir defendiendo ese discurso y nosotros vamos a seguir trabajando

de que la violencia terrorista vuelva a euskadi y porque este sea de verdad un lugar donde se honre los derechos humanos todo el mundo los practique y tengamos esa convicción moral compartida

en este parlamento y los demás foros saben que pueden contar con el trabajo con el compromiso

señor pastor usted habla desde el monopolio del sufrimiento el monopolio del sufrimiento pasado y las placas

de sufrimientos plurales de pluralidad de violencias y además de responsabilidades plurales que también a usted

desde el punto de vista del monopolio del sufrimiento pero es que además no se si me puede asegurar

no se va a repetir de nuevo en hechos luctuosos que podríamos tener ahora en el presente

la sociedad quiere pasar página demasiado rápido y dice que la paz es esto y a mí me da la impresión de que usted lo que quiere hacer es detenerse en el pasado

invertir muy poco en que mejore el presente un presente que no está completo un presente en el que todavía tenemos que seguir invirtiendo

pero es cierto que si hoy querríamos hablar de violencia o de terrorismo si se me permite tendríamos que hablar del presente del vigente

de esa expresión de violencia que todavía a día de hoy se mantiene la última y es la que se aplica a los presos y a sus familiares

única violencia que se mantiene hoy en día entiendo que el partido popular tenga

porque son precisamente con las políticas del gobierno español con las políticas del pp quienes obstaculizan quienes dificultan quienes sabotean

que una mayoría de esta sociedad empieza ya a interpretarlos como verdaderos enemigos de la paz entiendo que el pp quiera evitar el debate

de vencedores y vencidos que solo parece satisfacerles a ellos mismos

de la ponencia por eso prefieren tener en su mano

saboteando de seguirla dinamitando de seguirla obstaculizando desde fuera no vamos a aceptar vetos no vamos a aceptar imposiciones para hablar gu